beraz asentimentuz guztiok ados todos de acuerdo

egun on guztioi lehendakari sailburuok legebiltzarkideok el grupo socialista propone a esta cámara que

en relación al reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos en un contexto de violencia de motivación política

una tarea que quiero recordar que tiene un mandato unánime de esta cámara de marzo

con una sola abstención y ninguna otra oposición para entre otras cosas establecer las medidas normativas precisas para ese reconocimiento y reparación nadie ni incluso cuando eta no había cesado en su amenaza absolutamente nadie cuestionó esa necesidad

llevó al decreto del año dos mil doce que nos ha permitido reconocer a ciento ochenta y siete víctimas que lo son sin que se haya determinado

y nadie lo cuestiona tampoco ahora y es el que llevó a la ley que aprobamos en el año dos mil dieciséis bajo los mismos principios pero ahora sí hay quen quiere poner en cuestión en esa ley los socialistas aportamos

desde el cambio del título a la supresión de los apartados referidos al derecho a la justicia y distintas correcciones de redacción que pudieran impedir interpretaciones equívocas aun así es cierto quedaban algunas dudas y lo que hacemos hoy a esta cámara que como en los casos anteriores pensemos exclusivamente en las víctimas sin ninguna otra interpretación posible para hacer posible esas vías de reparación estamos obligados a hacerlo estamos obligados por el artículo quince de la constitución española que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes

cuando en un sistema democrático se vulnera ese derecho fundamental

no solo en la prevención de esas actuaciones sino también en su caso en su reparación y en su reconocimiento este parlamento es parte de esos poderes públicos y euskadi tiene competencias reconocidas para hacerlo y como continua esa misma exposición de motivos

asumir y reparar no es equiparar las acciones terroristas no justifican ni una sola vulneración que haya sido ejercida mediante abuso de poder pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos no puede tampoco ser presentada como un enfrentamiento entre dos violencias provocado por un conflicto político

a la atención de las víctimas que en su condición de tales no han sido reconocidas ni reparadas como tal sin ninguna otra interpretación posible y lo décimos expresamente

y de esto hablamos en la ley de víctimas de un estado de derecho que se fortalece

para construir una convivencia futura desde una memoria critica del pasado eso hoy no todos lo hacemos quienes proponemos esta ley sí lo hacemos

con el principio inequívoco de que jamás hubo una razón

ni para atentar contra la integridad de nadie aquí hay por tanto una voluntad política de reparar institucionalmente lo que es irreparable moral y personalmente porque es irreparable el sufrimiento padecido de forma injusta y porque la ley excluye expresamente cualquier denuncia que no hay prescrito que pueda seguir siendo reclamada ante donde debe

hay por parte de mi grupo un compromiso socialista con el estado de derecho ese que defendimos arriesgando nuestras vidas

el que venció a eta este que debe garantizar la integridad de cada ser humano

cuando es capaz de reparar cada vulneración de derechos humanos lo hacemos además desde la convicción de que en democracia la mayoría de los ertzainas guardias civiles policías nacionales y jueces han sido respetuosos con el estado de derecho

que fueron imprescindibles para acabar con medio siglo de vulneración de derechos humanos a cargo de eta también con las bandas que utilizaron a eta como excusa para sus crímenes y desde la reivindicación de que esos funcionarios públicos no merecen ser cuestionados

los sufrimientos que otros pudieron provocar que no merecen que cualquier denuncia pública que no se quiera sea utilizada por quienes todavía hoy cuando siguen sin reconocer lo injusta dolorosa e inútil que fue la historia del terror de eta pretendan alimentar inaceptables teorías del conflicto esta fue la razón que nos movió

dos mil once en el decreto del año dos mil doce y en la ley de dos mil dieciséis que ahora afinamos más para que esa reparación pueda hacerse posible creíamos sinceramente que el texto aprobado y mayoritariamente en vigor cumplía con las exigencias de máxima seguridad jurídica pero es evidente que quedaron dudas que eran las que tenía sobre la mesa el tribunal constitucional porque recordemos ese tribunal

para hacer esa reparación ni su necesidad lo que estaba estudiando era si quedaban resquicios que pudieran lesionar otros derechos como el de la presunción de inocencia

con el poder judicial y es verdad que esas dudas a pesar de todo podían quedar porque la ley como dijimos en su momento en este parlamento

promovido con voluntarismo pero falto de cocina de consenso que requiere toda norma o propuesta que mire a las víctimas mi grupo no se cansará ni en lo que respecta a esta ley ni a otras dolorosas cuestiones sobre nuestro pasado

máxima prudencia máximo consenso y máxima sensibilidad eso pasa por no intentar alimentar falsos agravios y por no alimentar promesas que este parlamento no puede atender porque no es competente para atender la reclamación de justicia ni determinación de responsabilidades

quienes estábamos en aquel pleno del año dos mil once y quienes no estaban volviéramos a coincidir en lo esencial personalmente me lo tomé como un mandato más que político moral porque me correspondió atender como consejera aquella petición parlamentaria y lo primero que hice fue visitar a esas víctimas olvidadas

empecé a entrar en aquellas casas a su espacio más privado en donde habían tenido que esconder su dolor para decirles que era nuestra intención rescatarles

porque no nos correspondía pero sí su necesidad de reconocimiento y reparación que iba a quedar claro que no hay nada por encima de la dignidad e integridad humana

de las fuerzas policiales para acabar con eta no puede ser cuestionada por los intolerables abusos de algunos pocos y ese es el camino que pactamos

las oportunidades y también las limitaciones con todos los grupos parlamentarios y con el gobierno de españa en el año dos mil doce por eso hoy hay ciento ochenta y siete familias

aquel decreto que trabajamos y que no fue recurrido fue un paso más en el recorrido para completar nuestra memoria

legalidad estado de derecho y consensos entre nosotros y entre los gobiernos de españa y euskadi la ley de dos mil dieciséis se concibió con la misma voluntad

dejaron de ser posibles hoy el gobierno de españa y euskadi vuelven a demostrar capacidad de entenderse y los grupos parlamentarios que los apoyamos damos cauce a ese entendimiento volviendo de nuevo los ojos a las víctimas sin dejar puertas abiertas

a injustos agravios entre quienes han sufrido el terrorismo o cualquier otra violación de sus derechos es lo que pretendemos hacer con esta reforma que hoy traemos a esta cámara
y para la cual pedimos el respaldo para la misma muchas gracias eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

eta bi gobernuek auziperatze dinamikari amaiera emateko borondatea adostu zuten el acuerdo alcanzado al que esta proposición de ley pretende dar cumplimiento busca reforzar las garantías jurídicas y constitucionales en realidad

las garantías que ya estaban presentes en el texto original de la ley primero la garantía de que no se invaden competencias reservadas al poder judicial y segundo que se garantiza el derecho al honor la intimidad o la protección de datos de terceras personas además

como es el reconocimiento y la protección de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos este es un cometido propio de todos los poderes públicos al que el estado hace caso omiso

las instituciones vascas sin embargo respondemos efectivamente las medidas de reconocimiento y reparación de víctimas pueden y deben ser adoptadas por los poderes públicos lógicamente siempre con límites y con el pleno respeto a los derechos fundamentales

y la compensación de las víctimas porque esto es lo importante las víctimas las víctimas son lo importante la comisión de valoración

y el hecho causante del mismo y en función de ese examen dictamina de modo favorable o desfavorable cada una de las solicitudes presentadas esta es una actividad claramente diferenciada de la depuración de eventuales responsabilidades penales por dichos hechos

que no lo constituya en su redacción inicial y que no lo constituye ahora

no altera el contenido ni el objeto de la ley no merma el compromiso de las instituciones vascas con las víctimas lo que hacemos es muy sencillo

para reforzar la seguridad jurídica y responder con mayor claridad a las críticas que desde algunos sectores se han realizado y se siguen realizando

y son más injustificadas si cabe en este momento con este doble objetivo se incorporan las siguientes modificaciones al artículo dos de la ley el ámbito de aplicación

se incluye una referencia a que la acreditación de los hechos ilícitos no podrá desconocer en modo alguno lo ya resuelto por la jurisdicción penal

se modifican expresiones de los preceptos para que no sea posible ninguna intromisión en la esfera individual de las personas que pudieran verse relacionadas con los expedientes que se tramiten se introduce un nuevo principio de preservación de la jurisdicción penal

de los poderes públicos vascos con los órganos del gobierno vasco encargados de la gestión del programa de la ley el objetivo

de los expedientes administrativos y se plantea todo ello para que no pueda entenderse que se vulneran competencias judiciales

a fin de que se suprima la llamada actuaciones de oficio de esta forma queda claro que la comisión actúa

de salvaguardar siempre los derechos al honor a la presunción de inocencia y a la protección de datos

queda claro pues también que la colaboración que reciba no contempla ninguna misión de esclarecimiento de hechos sino una exclusiva disposición para la más completa resolución de expedientes

estamos de acuerdo en una operatividad del programa que promueve la ley alejada de toda valoración del hecho que se aporte como soporte del hecho administrativo

y termino con la misma idea con que planteé con motivo de la aprobación de la ley

pongamos la mirada en las auténticas protagonistas las víctimas hoy un número importante de víctimas

un camino son víctimas de violaciones de derechos humanos por abusos policiales o para policiales entre mil novecientos sesenta y mil novecientos noventa y nueve

para avanzar en sus derechos a la verdad la justicia y la reparación sabemos y saben

que es cierto y desgraciadamente lo hemos podido comprobar estos dos últimos años sabemos y saben

e inaplazable un camino que será gradual o no será un camino que reiniciamos con la misma convicción que entonces

gracias presidenta lehendakari consejera consejero señorías buenos días

mi grupo quiere defender el voto en contra a la toma en consideración de esta proposición de ley que modifica la ley doce barra dos mil dieciséis y antes de hacer referencia a las consideraciones jurídicas queremos recordar que la citada ley doce barra dos mil dieciséis fue una ley muy mal hecha con prisas sin tiempo y además con advertencias de su falta absoluta de acomodo

a la constitución de acomodo constitucional podemos decir que esta modificación que se nos plantea hoy

constitucionales planteados en el recurso de inconstitucionalidad dos mil trescientos treinta y seis barra dos mil diecisiete se mantienen a nuestro juicio

trataré de indicar enseguida también queremos previamente llamar la atención sobre que no puede ser que una iniciativa de estas características suscite tanta oposición entre diversos colectivos como son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

hemos podido comprobar nosotros hacemos nuestra la protesta y entendemos que el reconocimiento de víctimas de delitos no puede ir de la mano de una ley autonómica en la búsqueda

este caso y este procedimiento utilizado a través de esta proposición de ley entendemos que estos tienen razón en su protesta algo falla en este planteamiento que esta proposición de ley hace y está claro la inquietud y graves reservas sobre lo que puede conllevar las previsiones de esta

de ley arranca del acuerdo del pasado treinta de julio entre la administración del estado y la administración de la comunidad autónoma vasca en la comisión bilateral pero no ha tenido en cuenta ese parecer negativo vuelvo a decir de los cuerpos

y las consideraciones de esta son de estas asociaciones

son de calado absolutamente legal de calado constitucional también lo son las que trataremos de realizar nosotros

que materializa dicho acuerdo de julio pasado supone un intento de desligar la comisión del hecho

hecho normalmente delictivo de la responsabilidad normalmente penal de su autor autores o quienes

exigiría ninguna responsabilidad bien se dice en el acuerdo de gobierno punto primero letra a que las modificaciones que se pretende incorporar

objeto de recurso de inconstitucionalidad y que han sido objeto de controversia ante el tribunal constitucional esto es una verdad a medias

pero no todos los recurridos específicamente de hecho en el fundamento de derecho primero se afirma que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

y mil novecientos noventa y nueve la interconexión evidente de todos los preceptos que integran la ley impugnada determina que el objeto de la impugnación no se circunscriba exclusivamente a algunos preceptos de la norma por más que tomados aisladamente pudieran

parecer inconstitucionales sino que se extienda a la impugnación de aquella en su totalidad en la medida en que parten de un mismo presupuesto inconstitucional a cuyo fin

consideraba que dicha ley esa ley doce barra dos mil dieciséis incurría

inmediata en relación con los artículos ciento diecisiete ciento dieciocho

lo que conlleva la vulneración de derechos fundamentales consagrados en los artículos dieciocho y veinticuatro de la constitución y por razones competenciales dentro del artículo ciento cuarenta y nueve determinados párrafos letras y apartados del artículo ciento cuarenta y nueve todos ellos también de la constitución del mismo parecer es el consejo de estado en el informe emitido sobre la ley doce barra dos mil dieciséis donde manifiesta que ha de subrayarse que aun cuando el objeto principal de la ley vasca no es la creación del referido órgano hablamos de la comisión de valoración

el establecimiento de la regulación necesaria para permitir la declaración de víctima de vulneración de derechos humanos a favor de las personas

se articula a través de un procedimiento cuya fase nuclear se asienta

a la comisión de valoración de las mencionadas funciones de investigación de delitos y determinación de su autoría incardinada según se ha razonado en la función jurisdiccional

ello determina que la impugnación deba dirigirse frente a la totalidad de la ley dada la evidente interconexión que existe entre todos los perfectos que le integran

preceptos de los que se infiere la naturaleza jurisdiccional de las funciones de la comisión de valoración para este grupo parlamentario

de ley resultan manifiestamente insuficientes en orden a la adecuación de la ley al marco constitucional contrariamente a lo que se asevera en la exposición de motivos de la propia proposición de ley y en relación con las exposiciones de motivos resulta significativo que se mantenga sin modificación alguna muy significativo que se mantenga después de esta modificación

que se mantenga sin modificación la propia exposición de motivos de la ley doce barra dos mil dieciséis

según se dice resultan tan sustanciales que transforman a la norma inicial en perfectamente constitucional de forma que el recurso planteado perdería

la exposición de motivos de la ley contiene principios y afirmaciones contrarias de la ley doce barra dos mil dieciséis contrarias a la reforma pretendida

determinando que la función principal de esta comisión se centrará a partir de la acreditación de los hechos en la valoración de los daños

de dichos hechos lo cual resulta imposible cuando esos hechos

consisten en nada más u nada menos que vulneraciones de derechos humanos con el resultado de lesiones secuelas daños

a pesar de las cinco modificaciones que se pretenden introducir la ley resulta que seguiría siendo e incurriendo en inconstitucionalidad en la medida en que mediante la comisión de valoración

propias de la jurisdicción penal en la investigación de hechos que pueden ser constitutivos de delito prescritos o no pero delitos es con todo ello la reserva de la función jurisdiccional de juzgar y hacer juzgar ejecutar lo juzgado contemplada en el artículo ciento diecisiete de la constitución

así como las consecuencias asociadas a la declaración de la condición de víctima implican

que pueden ser constitutivos de tipos delictivos siendo así el procedimiento para la determinación de las circunstancias o la autoría del delito aunque esté prescrito es susceptible de vulnerar el derecho

o el derecho a la presunción de inocencia sin que se posibilite que las personas afectadas puedan defenderse adecuadamente con las mismas garantías que en un proceso judicial

española y entre otras el derecho a ser enjuiciado por el órgano por el juez ordinario predeterminado por la ley y su correlativo derecho a la recusación del mismo

a la defensa o asistencia del letrado o el derecho a no declarar contra sí mismo

de inocencia por otro lado la ley doce barra dos mil dieciséis se aparta se separa de las normas que regulan otras ayudas a las víctimas cuyo reconocimiento derivado de unos hechos generadores

exige la tramitación de un procedimiento en el que se verifica la previa actividad judicial incluso cuando sin existir sentencia

procesos penales para el enjuiciamiento de los hechos constitutivos de posibles delitos así sucede por ejemplo en el ámbito del estado con la ley cincuenta y dos barra dos mil siete de veintiséis de diciembre por la que se reconoce

etcétera por ello conviene también dejar sentado la crítica que no se refiere a la existencia y regulación de un procedimiento administrativo para la declaración de la condición de víctima la comunidad autónoma del país vasco tiene competencia para regular ayudas

en el ámbito autonómico para atender a esas personas pero la cuestión aquí implica conflicto constitucional que ya hemos explicado

contempladas en la proposición de ley cabe apuntar el artículo uno de la proposición

de ley introduce en el artículo dos punto cuatro de la ley

en que se regula la forma de acreditar las vulneraciones de derechos humanos en un contexto de motivación

se propone la adición de algo obvio que no se puede desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal

defecto de resolución judicial por cualquier medio de prueba admisible en derecho sin que haya existido un proceso judicial previo

contemplando la constitución de una nueva instancia paralela a la judicial con competencias para apreciar violaciones de derechos humanos allí donde los órganos

hurtándose estos a su competencia reconocida constitucionalmente de juzgar cualquier presunta violación de derechos humanos en la medida

también el artículo dos de la proposición contempla por un lado la supresión

de los hechos que no conlleva eficacia alguna pues en realidad todo el articulado está trufado de referencias a expresiones tales

a efectos de demostrar acreditar testimonio de personas para su conocimiento directo e indirecto por los hechos dar cuenta del resultado de las investigaciones que ayuden

la comisión realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración es decir conocer acreditar demostrar investigar probar los hechos

que esclarecer los hechos algo que se quita en un artículo pero que se explica en todo el conjunto de la ley o algo muy parecido por lo menos

en el mismo artículo dos de la proposición se propone la adición

dos del artículo cuatro en la que se incluye el denominado principio de preservación de la jurisdicción penal en la investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de delito esto entra en contradicción no solo con la exposición de motivos de la ley que ya lo hemos dicho antes sino con el articulado de la misma en el que se contempla que la comisión de valoración solo suspenderá el procedimiento cuando se encuentre ante las actuaciones ilegales no prescritas es decir la comisión podrá determinar la existencia de hechos

que por definición siempre son actuaciones ilegales constitutivos de violaciones de derechos humanos no prescritas el artículo cuatro de la proposición de ley propone diversas modificaciones del artículo

doce barra dos mil dieciséis que dada la horrorosa técnica legislativa empleada es que hay que ver en la proposición de ley cómo se explica ese artículo cuatro y

legislativa lamentable a base de puntos suspensivos o de la expresión en una ley el resto igual es decir eso es un borrador pero eso no es una proposición de ley que pueda ser aprobada no se sabe qué es lo que se suprime con los puntos suspensivos no se sabe

si hay que meter más cosas qué es lo que pasa eso no es desde luego como técnica legislativa es absolutamente lamentable no se sabe qué es lo que se suprime y que es lo que se mantiene del texto original del artículo catorce es decir en concreto nos gustaría saber exactamente qué queda redactado

pues tal y como está redactado en la proposición tanto puede entenderse que se suprime la mayor parte del mismo como que se conserva en su integridad es decir esto ya por sí solo sería y es motivo para solicitar

lo que quiere decir basado en puntos suspensivos y en expresiones como el resto igual yo creo

alguien habrá hecho esa reflexión desde servicios jurídicos sobre todo de los partidos proponentes

llamativo por lamentable dicho artículo catorce regula la instrucción del procedimiento y resulta patente que a pesar de las modificaciones que se proponen se mantienen en el texto de la ley auténticas funciones de investigación de investigación coincidentes con las judiciales tales como la de grabar

de la administración solicitar información a otras administraciones o entidades públicas o privadas sobre datos antecedentes informes solicitar testimonios de personas

y tienen la obligación de comparecer en fin llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas en orden a la más completa resolución de los expedientes lo cual

antiguas diligencias para mejor proveer o diligencias finales propias de los procedimientos judiciales además el apartado siete del artículo catorce atribuye a la comisión con carácter exclusivo e independiente la facultad de proponer

este procedimiento supone la atribución a un órgano administrativo de competencias de investigación

aun prescritos y valoración de pruebas atribuidas por el artículo ciento diecisiete de la constitución española a los tribunales de justicia el apartado siete

un poder de naturaleza parajurisdiccional de la comisión para admitir o inadmitir denuncias solicitudes demandas de violaciones de derechos humanos valorar pruebas y proponer

a la comisión de valoración en una especie de comisión de la verdad paralela a la judicial que corre el riesgo de atentar contra los derechos fundamentales de las personas objeto de investigación

que a todos nos otorga el artículo veinticuatro de la constitución española y todo ello a pesar de las declaraciones o buenas intenciones contenidas en algunas de las modificaciones

resumen a pesar de las mencionadas modificaciones que se pretenden introducir en la ley esta continuaría en inconstitucionalidad por dos tipos de razones por una parte porque la ley doce barra dos mil dieciséis atribuye la comisión de valoración un carácter paralelo al jurisdiccional frente a ello el título

sus artículos ciento diecisiete y ciento veintidós junto a las reglas quinta y sexta del artículo ciento cuarenta y nueve punto uno consagran el principio de unidad del poder judicial y su configuración como un poder del estado lo cual

nunca de una comisión de valoración y la segunda que el estado tiene la competencia exclusiva para su regulación y por otra parte la ley

de vulnerar a través de su aplicación los derechos fundamentales protegidos en los artículos dieciocho de la constitución

judicial efectiva en este aspecto es cierto que la reforma contemplada en la proposición suprime la previsión inicial de difusión por los poderes públicos

de que la comisión de valoración haya considerado vulneración de derechos humanos producidas

y catorce punto ocho pero no es menos cierto que a pesar de lo proclamado en el artículo cuatro y catorce de la proposición los derechos fundamentales a la presunción de inocencia

de la intervención preceptiva de la administración de justicia como órgano depositario en exclusiva de la facultad de investigación reconocimiento reparación de las actividades de naturales jurídica como sin duda son las violaciones de derechos humanos

son objeto de vulneración señoría mi grupo ha analizado esta proposición

y ha querido utilizar este turno a modo de enmienda de totalidad no es un proyecto de ley sabemos que este trámite es el de la toma en consideración pero hemos entendido que esto nos tenía que servir

política al principio en relación con la sensibilidad o la no sensibilidad de los grupos proponentes en relación con las dificultades que tenía

esta proposición de ley como lo tuvo la ley doce barra dos mil dieciséis de la que hemos hablado antes y por eso hemos planteado y hemos entendido que teníamos que oponernos es decir lógicamente si se admitiera a trámite también nuestras enmiendas como hicimos con mala suerte con la ley doce barra dos mil dieciséis donde el procedimiento legislativo se hizo sin plazos con prisas sin ampliación de plazos en tiempo record sin análisis

que hemos hecho este planteamiento de enmienda a la totalidad ahora lo haremos también en nuestras enmiendas parciales muchas gracias

la verdad es que escuchado al señor barrio en su intervención lo primero que se me ha venido a la cabeza escuchándole es con qué partido popular

el decreto aquel año dos mil doce porque fue un partido popular con el que

en su seno una comisión de valoración comisión de valoración que por otro lado debo decirle señor barrio que es un órgano administrativo y que cualquier ejecutivo necesita los hechos fehacientes evidentemente para declararlo víctima porque si no

sin ventanilla que cualquiera que se acerque y diga que lo es el gobierno automáticamente sin ninguna cuestión jurídica ni procedimental proceda al reconocimiento y resarcimiento de la víctima hombre no esto es un ejecutivo

y lógicamente tiene que existir la parte de la prueba por eso la comisión de valoración de la ley

del año dos mil doce una comisión de valoración que reciba a la víctima la escucha aporta documentación la que tenga y se trata de acompañar esa documentación con más documentación que efectivamente diga que aquella víctima lo es

por los trámites internos a declararla víctima y a proceder a su reparación es que es la seguridad jurídica es que la administración no puede hacer otra cosa y en eso estamos y además usted ha hecho un cuestionamiento global de la ley cuando ni siquiera el constitucional ha cuestionado la ley no ha cuestionado que tengamos competencias para hacerlo porque usted se ha centrado que parece que todo el objeto de la ley es la creación de una comisión de valoración

es el resarcimiento y reconocimiento de las víctimas ese es el objeto de la ley y lo hacemos desde las competencias que tenemos como comunidad autónoma en el campo de lo social

dos mil dieciséis debo recordarle que ustedes no cuestionaron en ningún momento que hubieran existido abusos no cuestionaron que tuviéramos estas competencias estoy hablando de las enmiendas que enmiendas que presentaron ustedes entonces ahora si en este trámite ustedes presentan otras es legítimo cambiar de opinión pero me estoy refiriendo a cuanto este debate se suscitó en esta cámara

y también ahí comparto con usted hay que limpiar cualquier sospecha o

invadir el ámbito judicial por lo tanto ese es también el objeto de lo que hoy presentamos en esta cámara decir que hay que dejarlo bastante claro usted ya

ha rizado el rizo porque realmente señor carmelo barrio usted no es nuevo en esta cámara hemos compartido muchos años algunas ponencias de leyes

hacía alusión a técnica legislativa a los puntos suspensivos hombre quiero decir usted tiene el texto de la ley aprobado en esta cámara tiene las enmiendas

partido nacionalista vasco y el partido socialista y no tiene más que hacer el trabajo quiero decir se ha hecho en muchas ocasiones es fácil de leer en fin no sé igual porque yo tengo

formación jurídica pero no es tan difícil ni tan complicado situar los puntos suspensivos y el resto sigue igual creo que debiéramos de ser capaces de establecer argumentos de mayor peso porque creo que lo que se debate hoy en esta cámara y lo que vamos a aprobar en los próximos meses con esta

es algo tan serio como sacar del olvido a personas que han sufrido vulneración de derechos humanos y yo que represento a un partido

creo que el estado de derecho como mejor se defiende es depurando sus propios errores y si el estado no lo hace pues lo hacemos desde la comunidad autónoma en este campo que es tratando de compensar y reconocer a las víctimas y como hay grupo que no han intervenido en este turno y lo harán en la explicación de grupo

que a diferencia de otras comunidades autónomas nosotros aquí nos hemos guiado por el sentido de la utilidad de la ley buscamos el reconocimiento de las víctimas y no hacer bonitos discursos que al final terminan en frustraciones el grupo socialista jamás trabajará

que lo que busca es reparar a las víctimas y también quiero hacer a los estándares democráticos de españa porque en estos últimos días se ha cuestionado el poder judicial se han cuestionado desde algunos partidos políticos y quiero decir y destacar que españa participa de organismos internacionales y del tribunal de

interno y que lo hace voluntariamente y que además es de los estados que menos sentencias y asuntos llevan al

ante el tribunal de estrasburgo y no todos fueron condenatorios
mientras que italia alemania o francia italia llevó treinta y siete amaitu mesedez alemania dieciséis o francia doce lo cual dice mucho de la calidad democrática de nuestro estado de derecho y esta ley que hoy discutimos aquí contribuye también a ello eskerrik asko

señor barrio no voy a entrar ya sabía yo que íbamos a volver otra vez al procedimiento de la tramitación de la ley en el año dos mil dieciséis

constitucional que cuando un organismo o una cámara

al fondo de la cuestión de los hechos y yo creo que ese es el argumento al que usted se agarra en todo caso usted ha dicho que en aquel trámite se hicieron numerosas advertencias

que vinieron a esta cámara ni tan siquiera por los que vinieron a propuesta del partido popular como

o el entonces fiscal superior del país vasco

de algunos colectivos protestas y criticas absolutamente injustas

señor barrio pero las críticas de personas o colectivos a las leyes no invalidan el valor de las mismas si no toda la producción legislativa

en la calle y en la academia como la de los gobiernos del partido popular

ha querido deslizar no creo que voluntariamente una pequeña trampa diciendo que no solamente los artículos

han sido recurridos sino toda la ley como si el recurso

se pronunció suspendiendo solamente se prescindió

cautelarmente solamente unos artículos de la ley los que se vienen a modificar y no toda la ley podía haberlo hecho y no lo hizo por lo tanto

juzgados en todo caso todos los expertos que pasaron por la comisión del parlamento

la legalidad la procedencia y las competencias de la comunidad autónoma vasca a prestar

averiguar y fijar los hechos delictivos le corresponde al poder judicial es que eso no lo ha discutida nadie ni los promotores de la ley en el dos mil dieciséis ni ahora ni en ningún momento y lo hacen dentro del proceso penal pero esto y lo ha explicado perfectamente la señora mendia no debe confundirse con

o sanitaria y con el trabajo en el seno de la comisión de valoración una cosa es que la comisión de valoración

y otra cosa muy distinta es el esclarecimiento judicial de los hechos la ley expresamente lo está negando tenemos obligación obligación legal de acometer este trabajo de acometer esta responsabilidad a la que el partido popular no seé por qué siempre se pone de costado por razones de fondo por razones de procedimiento o por lo que sea

a las personas que hubieran sufrido lesiones graves o daños en su salud como resultado directo de un delito intencional de violencia y que esa indemnización se concederá incluso si el autor

en el artículo nueve dice literalmente una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado aprendido juzgado o condenado y si no fuera así

cuya autoría es dudosa nunca habrían visto resarcido sus derechos nunca

un reconocimiento o una reparación por lo tanto yo creo que el problema no son aspectos técnicos el problema es la falta de voluntad política en hacerlo hay un mandato legal en atender el reconocimiento y reparación de las víctimas hay un mandato moral existen o no han existido esas víctimas señor barrio existen o no las víctimas a las que pretende dar reconocimiento o reparación esta ley tienen o no derechos estas víctimas a ser reconocidas o reparada

pueden ustedes mirarles a la cara y decirles que no existen esas víctimas y que no tienen esos derechos

ustedes creen que existen y que tienen esos derechos con esta ley o con otra

en un proceso de reconocimiento o reparación por qué no lo han hecho si no quieren hacerlo en este por qué no lo han hecho durante las décadas que ustedes han estado gobernando en el estado español han estado ustedes en la presidencia del gobierno de españa por qué han renunciado al cumplimiento de la ley de las obligaciones que tienen los poderes públicos con las víctimas

el problema es un problema de falta de voluntad política de falta de reconocimiento y de compromiso con estas víctimas y en eso ustedes han avanzado poco en todos estos años eskerrik asko iturrate jauna

siempre trata de llevar el discurso en estas cuestiones hacia un planteamiento contrario al partido popular

siempre le hemos dicho y siempre se lo repetimos y él se niega a entenderlo y lo utiliza después en su contra siempre le hemos dicho que nosotros no cuestionamos nunca lo hemos hecho parece mentira que vuelva otra vez

a todos nosotros en relación con este tema y siempre nos repite lo mismo si nosotros no cuestionamos el derecho al resarcimiento de la víctimas nunca lo hemos hecho a las víctimas de los derechos nunca lo hemos hecho

no décimos ni nos negamos a que sean indemnizadas por supuesto que no no no nos negamos eso sí qué hacemos nosotros qué hacemos nosotros eso que usted dice cuestiones de técnica jurídica no cuestión de técnica

constitucionales de amparo constitucional y si no lo hacemos nosotros es que no lo hace nadie señor iturrate y por eso tenemos esa obligación

seguro que hay fórmulas para este

seguro que hay fórmulas en relación con las víctimas de los delitos en relación con las

pero nosotros hemos visto que este no es el instrumento pero por qué pues porque hemos identificado desde nuestro punto de vista alguien lo dilucidará en su momento

y por eso nos hemos opuesto no porque nosotros hemos puesto de manifiesto la dificultad que este texto tiene y no es baladí las incorrecciones jurídicas no son baladís

puntos suspensivos y bueno y lo demás queda como está no no eso no se puede decir en un texto de estas características y también porque nos han planteado dudas la comisión de valoración porque esta modificación a nosotros no nos resuelve las dudas

desaparece el tema del esclarecimiento de los hechos como definición pero toda la ley

es decir ese es el elemento fundamental es decir es que hay una oposición jurídica en relación con este proyecto de ley como la hubo en relación con el proyecto de ley anterior

mire señora mendia y usted ha dicho además que hubo un debate

de la legislatura pasada que mire no hubo ningún debate

el trámite y el procedimiento en relación con el análisis del proyecto de ley el proyecto de ley

y aquí el rodillo en ese caso de la mesa y el rodillo

parlamentarios hizo que no hubiese ni lo que suele ser normal

una ampliación de enmiendas son textos complicados jurídicamente una ampliación de enmiendas un análisis sereno un trabajo en ponencia se simplificaron los plazos

una vez de que se tome en consideración de si se respeta un poco más que en ese caso

el trámite legislativo pero sí señora mendia lea usted el artículo catorce

de una manera clara tampoco me ha dicho nada

un buen momento para decirme que le parecen a usted las protestas la posición también jurídica también sindical o también

profesional en relación con los que han hecho una protesta

todos los días lo estamos viendo en relación con esta modificación con la ley doce pero también con

las reservas que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a través de asociaciones o sindicatos y los principales colectivos de víctimas del terrorismo también están haciendo en relación con esta circunstancia incluso algún sindicato de la ertzaintza me gustaría saber su opinión porque yo creo que es relevante también

cualitativamente es relevante y no nos ha dicho nada y a nosotros sí que las hacemos nuestras entendemos

manifiestan preocupaciones que se ajustan al derecho manifiestan preocupaciones que se ajustan a la ley

también hemos tratado de explicarnos antes sobre esta cuestión

en esa técnica descalificatoria al final

está la descalificación hacía el partido popular hacía sus posiciones al señor iturrate le irrita que tengamos una posición jurídica una posición constitucional

eso no les sirve de excusa para acusarnos de que nosotros no sé qué no queremos hacer

porque cuando nos hemos opuesto a alguna de sus iniciativas

justificadamente con fundamento y además se ha dado la razón porque se han establecido recursos y andadura jurídica en relación con la neutralización y la impugnación de alguno de los artículos de esa ley o sea que nosotros hemos tenido razón de alguna manera y la seguimos teniendo seguramente porque

esa ley doce barra dos mil dieciséis que sigue el mismo camino con las pinceladas jurídicas que ustedes han hecho en la modificación y que nosotros hemos tratado de explicar

de que esa ley que en teoría iba a ser en la búsqueda de los consensos

en que no hubiese debate de esa ley en que se acortasen los plazos en que no hubiese ponencia

más periodo de enmiendas usted no pidió al gobierno celeridad para preservar

a la orden del gobierno de hay que aprobar esta ley como viene y punto o sea

en hacer argumentaciones y una vez más usted ha faltado a la verdad porque usted se queda con lo que quiere usted dijo que en el trámite de audiencia del proyecto de ley doce barra dos mil

aquí hubo consideraciones de muchos tipos no simplifique no simplifique

dice que tenía que decir no quiere decir que no fuese y que alguno hablase bien claro en relación

usted se olvida de lo que quiere además hubo dos informes en esa ley

uno del ministerio de justicia y otro del ministerio del interior que hablaban de la inconstitucionalidad de la posible inconstitucionalidad de esos preceptos legales es decir señor iturrate o sea sea un poco más amplio

que usted no tiene razón cuando los que comparecieron aquí pusieron serias reservas en la legalidad o en los problemas que esa ley iba a acarrear pero en cualquier caso

una ley loable se puede convertir en algo perverso una ley una idea loable se puede convertir en algo perverso nosotros no queremos

que le hagan ser antijurídica o que le hagan ser inconstitucional habrá que buscar las fórmulas somos políticos somos parlamentarios también está el congreso

hay unas nuevas mayorías yo creo que se pueden ejercer no en ese sentido yo le insisto a que hagan una reflexión sobre lo que nosotros entendemos que es una incorrección en este caso de la ley la trataremos y la debatiremos presentaremos nuestra enmienda

y jurídicamente yo lo fundamentamos en la falta de acomodo constitucional

batzuk zituzten eta ondorio horiek biktimak dira señor barrio cómo me mira usted a mí y no

hay una película clásica que me recuerda el debate de hoy el increíble hombre menguante

expectativa de esclarecimiento a las del estado se extirpa incluso ese término ese término del texto anterior que se aprobó en este parlamento mientras a las víctimas de eta se les pone un fiscal para reabrir casos

están cerradas y prescritas se les dice tranquilos nadie

ante sus gravísimas responsabilidades con este cepillado de la ley se ha buscado más aplacar y apaciguar a asociaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

se ha mostrado más proximidad a los perpetradores que a quienes sufrieron sus gravísimas vulneraciones en esta gestión ha preocupado más el honor de los delincuentes de estado que la dignidad de sus víctimas y con esta ley era palmario hoy queda más claro aún que habrá torturados pero no hay torturadores que hay ejecutados pero los ejecutores son impunes y están encubiertos

siguen sueltos y como todos sabemos recompensados condecorados y ascendidos francamente echo de menos una respuesta institucional gubernamental más contundente contra esas asociaciones de policías sindicatos de fuerzas de seguridad y del estado incluida la ertzaintza que ayer se manifestaban

para negárselo a otras precisamente a las víctimas que ellos mismos victimizaron echo de menos que se ponga pie en pared ante aquellas amenazas con recurrir

si las posiciones negacionistas de la existencia de algunas víctimas o de los derechos que tengan hubiesen venido de otro signo pero efectivamente parece que pesa más no soliviantar

bajo la disculpa de reforzar las garantías jurídicas y afianzar la constitucionalidad

proceso legal es decir que no hay un camino para las víctimas del estado para obtener justicia y que deberán seguir luchando contra viento y marea contra todos los elementos para que sus derechos se vean reconocidos

aparece profundamente trastocado el voto favorable no es a la ley

rebaja y el voto contrario no es a su rebaja sino a que exista una ley que ampare

a que estas tengan una reparación institucional y ahí

cómo se trastoca profundamente el voto eh bildu se abstiene porque aunque nos oponemos

pesa sobre nosotros la necesidad de que las víctimas del estado comiencen a ser reconocidas incluso en esas condiciones absolutamente injustas discriminatorias y adversas que se pueda comenzar a dar verdad a tantas víctimas hoy olvidadas termino

no defraudaremos esta expectativa no podemos cerrar ese camino por responsabilidad si bien dejando clara cuál es nuestra oposición frontal en fondo y forma

a nuestro entender los chicos y chicas menores de edad acceden hoy con demasiada facilidad a estas

hoy en día apostar es sencillo es accesible y lo peor de todo no está estigmatizado el juego patológico

sino una adicción en el juego hay dependencia en el juego hay tolerancia y síndrome de abstinencia

son accesibles porque a pesar de que existen locales exhaustivos para la instalación de estos terminales es cierto que el mayor número de apuestas se realizan en locales de hostelería en bares es accesible porque a estos establecimientos no existe ningún tipo de control para que los y las menores

pues si no existe control impulsémoslo y porque cada vez tenemos más terminales de este tipo a nuestro alrededor en diez años

y como decía más de la mitad se encuentran situadas en bares

y no olvidemos que en muchos casos estas máquinas son la puerta de entrada a la ludopatía

que apostar no está mal visto hoy en día no está estigmatizado

de los riesgos que conllevan este tipo de conductas hoy en día la sociedad da muy poca importancia al hecho de apostar por tu equipo entre amigos en una máquina cualquiera

problema no somos conscientes de que estamos ante unos comportamientos adictivos como decía no somos conscientes ni de que estamos ante un problema de salud pública yo sé que la consejera de seguridad está siguiendo el debate atentamente pero creemos que aquí es necesaria la implicación de otros departamentos

de salud pública y si no se es consciente de esta realidad pues hagamos lo posible por concienciarnos

cigarrillos fotos absolutamente explicitas donde nos dicen fumar mata todos y todas identificamos el tabaco como un elemento

a través de una activación de control remoto y si se es mayor de edad pues lo puede hacer con total libertad pero siendo conscientes de lo que compramos

ahora en esta foto es una máquina de apuestas deportivas si eres menor no aceptes el reto aquí no dice

jugar es malo aquí dice es un reto

todo lo contrario qué más quieren los menores hoy en día que les pongamos un reto encima de la mesa

este tipo de mensajes jaun andreok adikzio legearen

pedimos que se estudie la posibilidad de que estas máquinas tragaperras y de apuestas deportivas situadas en bares

a través de un mando exactamente igual que se hace con las máquinas expendedoras de tabaco gracias a esta medida nos aseguraríamos de que los y las menores no accediesen con la facilidad que hoy en día lo hacen a estos terminales neurri hori izan daiteke edo beste bat nortasun

ludopatien kalteak besteak beste además no olvidemos que las campañas publicitarias para enganchar a los chicos y a las chicas son sumamente agresivas nos bombardean con anuncios que nos incitan a hacer apuestas

protagonizados por personajes conocidos o referentes en el mundo del deporte alimentando ese binomio apuestas deporte

ídolo durante algunas retransmisiones en directo se anuncian plataformas de juego o apuestas y en las redes sociales desde cuentas

se anima a apostar por eso entre otros motivos durante los seis últimos años el número de personas afectadas por el juego se ha multiplicado por cuatro las apuestas deportivas es el juego que más se ha incrementado tenemos una encuesta

de dos mil doce a dos mil diecisiete la frecuencia de las prácticas de apuestas deportivas se ha incrementado de un uno coma seis

abordar una iniciativa que afecta al control y al uso de máquinas para hacer apuestas y de máquinas tragaperras desde elkarrekin podemos ya mostramos

en relación a las medidas que desde su departamento y desde el gobierno vasco se van a poner en marcha para proteger a la población más vulnerable fundamentalmente en niñas niños y jóvenes ante el aumento de salas salones y espacios habilitados para el juego

en diferentes recintos hosteleros en nuestra intervención pusimos sobre la mesa datos con los que contamos a día de hoy aunque si bien

realizar estudios y diagnósticos de la situación actualizados las cifras que se manejan son demoledoras y el panorama desolador estamos viendo

está aumentando notablemente el número de salones de apuestas y con ello el número de personas con problemas con la ludopatía en euskadi que asciende ya

y que aumenta especialmente entre los jóvenes de dieciocho a veinticinco años donde en los últimos cuatro años ha pasado de seis por ciento a un veinticinco por ciento

que el veintiséis por ciento de la población vasca es jugadora activa esto es que ha gastado dinero al menos una vez a la semana durante el último año

y en este escenario de cifras desorbitadas desde las asociaciones y colectivos que luchan contra la ludopatía y las adiciones derivadas del juego en euskadi alertan de una situación que expone a las personas a las más jóvenes a un peligro del que es muy difícil salir la ludopatía es un trastorno reconocido por la organización mundial de la salud sus consecuencias son alarmantes no solo para la persona que la padece sino para su entorno familiar y profesional estos mismos colectivos apuntan

que se acercan a pedir ayuda y que son jugadores y jugadoras mucho más jóvenes que antes denuncian además que ya han llegado

con problemas de adicciones en las apuestas deportivas así como muchos padres y madres de menores para solicitar ayuda al encontrarse boletos en los bolsillos de sus pantalones la proliferación de la oferta del juego on line ha llegado también

salones de juego en lugares de especial sensibilidad en las cercanías incluso de centros escolares e institutos públicos con la consiguiente exposición de las alumnas y los alumnos al juego y a la normalización de una actividad que puede desembocar

a esto hay que añadir también que en euskadi se permite instalar máquinas de apuestas deportivas en los bares as los dueños de los salones alquilan un local

mejor si es un bar de los de toda la vida cobrándole un alquiler simbólico

aunque en realidad el dueño le exige al hostelero precios populares acciones con cervezas baratas

y un horario amplio porque de alguna manera quieren que pasen allí el mayor tiempo posible aun teniendo perdidas porque el negocio no es el bar sino el juego el fin último pasa por convertir las apuestas en algo social en algo normalizado si consigues integrar las apuestas en la vida social

solo y esto es algo que nos preocupa muchísimo a nosotras además la preocupación principal de asociaciones y psicólogos que combaten las adicciones está en el acceso de los jóvenes a las apuestas

en jugadores descontrolados los chavales de menos de dieciocho años entran en las casas de apuestas y en los bares con máquinas y nadie

nada hay que tomar medidas que controlen esta situación y estudiar las posibilidades para que los menores no tengan un acceso ilimitado a estas terminales en las puertas de los colegios

de empresas y casas de apuestas deportivas y como ya hemos reiterado en nuestro discurso no es difícil encontrar estos establecimientos cerca de un centro escolar ante esta situación colectivos y asociaciones de vecinos van para variar por delante de las instituciones y ya se han manifestado

ante la avalancha de máquinas y apuestas y aperturas de salones de juego muy cerca de colegios y parques infantiles por ejemplo

ha presentado quejas ya que se ha situado el salón de juegos muy cerca de una de las ikastolas les preocupa que los niños puedan normalizar este tipo de ocio no les gusta que el salón de juegos se haya instalado en el barrio y menos que lo haya hecho frente a un centro educativo el hecho de que niños y niñas

puede llevar a que normalicen este tipo de locales y que la gente acuda a ellos lo que es

por ello uno de los dos puntos de la enmienda que hemos presentado habla de estudiar la posibilidad

de apuestas deportivas y máquinas tragaperras en las inmediaciones de centros escolares culturales juveniles y otros similares que puedan requerir protección derivada

de sus usuarios no nos parece una medida desproporcionada nos parece una medida concreta que puede solucionar y puede ayudar a que

de euskadi no vean el juego como algo completamente normalizado a este juego presencial hay que sumar

y en el que además el adolescente si consigue acceder disfruta de un completo anonimato y es difícil no sucumbir

en plataformas digitales y medios de comunicación nos bombardean constantemente con la promoción de las casas de juego y empresas

copan espacios publicitarios con las caras más populares del momento y utilizan a los ídolos deportivos para despertar en personas cada vez más jóvenes

la posibilidad de probar suerte seguramente todas ustedes hayan visto un anuncio protagonizado por un presentador de origen vasco y larga trayectoria y prestigio en la televisión estatal que cede su imagen para que miles de jóvenes vayan a engancharse a las casas de apuestas y que con un lenguaje repetitivo y agresivo incita a apostar

compulsiva estos anuncios llevan a cientos de personas a convertirse en ludópatas y evidentemente a sus familias a caer en la desgracia

las patrocinadoras principales de muchos equipos deportivos diecinueve de los veinte equipos de la liga de futbol de primera división tienen algún acuerdo con empresas de apuestas para su patrocinio al igual que pasa en otros deportes como el baloncesto además las instalaciones deportivas y estadios de los equipos vascos

que incitan directamente a las aficionadas al deporte a apostar sin avisar del peligro que esto supone parece que importa más el negocio lucrativo que la ética en horario infantil no se permite sin embargo que los deportistas ni nadie promocionen el alcohol o el tabaco sin embargo con el juego hay mucha más manga ancha por ello

en materia de regulación de publicidad sí está en sus manos y por eso lo solicitamos en el primer punto de nuestra enmienda establecer limitaciones de publicidad promoción y patrocinio

a las apuestas deportivas en los medios de comunicación públicos de la comunidad autónoma de euskadi en actividades institucionales que cuenten con financiación pública o que se realicen haciendo uso del espacio público y en terrenos o estadios deportivos así

además una de las peticiones de asociaciones y colectivos

en marcha más campañas de sensibilización y se incluya la información sobre las consecuencias negativas del juego en campañas escolares sobre adicciones

con las asociaciones y colectivos del sector es importante para elkarrekin podemos avanzar en esta materia y destinar más recursos a campañas

para nosotras esta iniciativa es una oportunidad para que defendamos los derechos de las personas más vulnerables a caer en las consecuencias negativas del juego a través de la prevención y de la aplicación de pequeñas medidas de control y campañas de sensibilidad de cara a la sociedad frente

de algunas empresas del sector por lucrarse y obtener beneficios sin importar las nefastas consecuencias de un uso irresponsable mila esker

señora presidenta señorías compartimos con la proponente de la iniciativa con la señora blanco la preocupación por las adicciones por la

por lo tanto nos parece razonable que tantas veces como lo consideremos oportuno podamos debatir a este respecto

sobre las adicciones prevenir sobre ellas establecer aquellas medidas de prevención de cautela de información de asesoramiento de atención para que las personas no caigan en

con especial hincapié y con especial interés esto tiene que referirse a los menores de edad es decir a esa población de riesgo que existe en el país vasco como en todas las sociedades que está en aquellas personas a las que se les ha prohibido el juego fundamentalmente por esa pero también en aquellas que pueden acceder por primera vez porque van viendo comportamientos en la sociedad

invitando a ello considero que los poderes públicos son la vanguardia del trabajo

los únicos que estamos convocados a ello creo que es muy difícil resolver el acercamiento a una de juego o de consumo de una sustancia o de cualquier otro tipo si en el lugar de mayor referencia e influencia

existen esos comportamientos cuando

probablemente tiene poca influencia en ese joven el boletín oficial del país vasco y sin embargo tiene mucho

aquellos comportamientos que ve a su alrededor por lo tanto la lucha contra las adicciones es una responsabilidad de los poderes públicos pero es también un ejercicio de autocrítica

ayudar a que esto no sea visto por los jóvenes como muchas veces se ve el juego una salvación un divertimento un estímulo en fin comportamientos que son muy usuales en nuestras calles a diario en fechas señaladas por lo tanto compartiendo con la proponente la necesidad de seguir profundizando sobre esto también hay que advertir que en el país vasco desde hace muchísimos años hay herramientas instrumentos que permiten la lucha contra

y también como ya se conoce con sustancias hay leyes hay decretos hay órdenes recientemente se celebró

la comisión de salud en la que se planteó entre otras cosas resoluciones a este respecto dentro del plan

de lucha contra las adicciones para los cuatro años a partir de que se

dos mil veintiuno es decir hay herramientas hace unas pocas fechas en el mes de octubre el día dieciséis el gobierno vasco

el observatorio vasco del juego y ese observatorio entre otras cosas va a permitir abordar y tratar sobre todas las tareas que hoy aquí se tratan y que están reflejadas en la voluntad

los presentes tanto de los que han hecho la iniciativa como de los enmendantes como de los no enmendantes creo que la lucha contra las adicciones es un elemento unitario en esta cámara es una política trasversal no creo que tenga una ideología

sino que es parte de una unidad de un consenso que yo espero que se siga manteniendo en el tiempo más allá de cómo se resuelva este debate yo creo que las diferencias principales entre lo que nos propone la autora de la iniciativa y lo que hemos presentado otros

si se profundiza ahora mismo en tareas concretas si se da un plazo

avanza desde el observatorio en una visión más general tocando todos los campos y llegando a aquellas medidas concretas particulares que posteriormente desde ese observatorio con la concurrencia de distintos departamentos y con la concurrencia de expertos crean oportuno

ahí la diferencia una diferencia que además también tiene su abordaje en otra iniciativa y en otro escenario

dentro del campo de la salud próximamente bueno yo creo que como decía tenemos herramientas tenemos preocupación tenemos

en relación a poder atender fundamentalmente a las personas con más riesgo y más vulnerables ante

ante el juego ante las apuestas ante todo este tipo de

a una vida feliz que normalmente lleva a una vida de frustración y a una vida de fracaso y por lo tanto la responsabilidad pública es la de poder atenderla poder evitarla poder prevenirla y en eso yo creo que estamos todos por lo tanto pienso

las votaciones creo que hay que preservar ese espíritu unitario ese trabajo unitario que antes o después

de una forma más específica o de una forma más generalista creo que nos va a dar frutos muy similares muchas gracias eskerrik asko prieto

bat dugu gaur eztabaidagai es cierto como

realidad emergente en cuanto a las nuevas conductas y patrones asociados a las tecnologías digitales que tienen su ámbito claro también en el juego internet y otras tecnologías de la comunicación e información han hecho que los juegos de azar hayan sufrido una evolución

nuevas plataformas de juego cuyas opciones son muy variadas y además están en evolución constante sarbiderako erraztasun horren ondorioz gero eta

dos mil diecisiete ya recoge como ha apuntado la señora blanco que si bien las apuestas deportivas son

de estos juegos de llegar a generar adicciones en este sentido coincidimos con el resto de los grupos en la necesidad de avanzar en reforzar la prevención

sin sustancia a estas nuevas adicciones comportamentales cierto es y también se ha hablado hoy aquí que el gobierno vasco lleva ya tiempo dando pasos para adecuarse a estas nuevas

se incorpora la normativa vasca con vocación de integridad además de las drogodependencias de adicciones a sustancias las adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia

patológico ludopatía y a las conductas excesivas en el uso de las tecnologías digitales contamos además con un nuevo plan de adicciones al que ha hecho también referencia anteriormente como un instrumento de planificación ordenación y coordinación de las estrategias e intervenciones que se desarrollen en euskadi en el ámbito de las adicciones y también se hace referencia específicamente

sin sustancia disponemos además de una normativa específica de juego muy detallada y que se ha ido adaptando a un sector como el juego que está en constante evolución una normativa que aborda de manera global y sistemática la actividad del juego estableciendo las reglas básicas o de las que tiene que sustentarse la ordenación de estas actividades en este sentido el reglamento general del juego

y la actualiza conforme a las actuales exigencias normativas adaptándose a la evolución del mercado a los cambios tecnológicos y a la aparición de nuevos canales de juego

una normativa que además establece límites cuantitativos en cuanto al número máximo de autorizaciones máquinas elementos o sistemas de juego locales autorizados

distancias entre locales regula específicamente además la publicidad

además desarrolla e impulsa las medidas que con el fin de prevenir situaciones de juego problemático o juego patológico contempla la ley de

medidas para proteger especialmente a las personas menores de edad y a los colectivos más vulnerables y para salvaguardar los derechos de las y los participantes en el juego para el cual regula el estatuto las personas jugadoras

euskadi además se encuentra a la vanguardia estatal en lo que al control y vigilancia del correcto desarrollo de las actividades propias del juego se refiere de hecho la ertzaintza cuenta con una unidad policial específica dedicada a esta cuestión la unidad de juego y espectáculos y precisamente por la importancia

en esta cuestión en concreto y por lo que a los menores de edad específicamente se refiere desde el departamento de seguridad se vienen articulando mecanismos de colaboración y criterios de actuación tanto dentro de la propia ertzaintza como en colaboración con las policías locales en cuanto a posibles vulneraciones por parte de las o los titulares de locales de juego o que cuentan con máquinas

regulación concreta y detallada del sector de juego y de que además las adicciones sin sustancia

de prevención y atención compartimos como he dicho también antes totalmente la preocupación por esta nueva realidad una realidad compleja y cambiante que requiere reorientar las políticas públicas de prevención y atención sin ninguna duda pero creemos que estando de acuerdo con los principios que inspiran su iniciativa señora blanco debemos de abordar esta realidad analizando desde lo global y terminando

plantean ustedes esta iniciativa en el fondo podemos estar de acuerdo estamos de acuerdo pero no en la forma en el método para alcanzar un objetivo

compartimos y en este sentido señora blanco no podemos apoyar la iniciativa que hoy ha presentado

creemos que antes de dar pasos concretos con la adopción de una medida concreta determinada

hacer previamente un análisis de la situación que será la que permita valorar

el tipo de actuaciones que se tienen que poner en marcha de manera más efectiva para los objetivos que se pretenden

son múltiples los canales de acceso a las apuesta a los juegos

a través de diferentes vías es una realidad como décimos amplia y compleja y en este sentido

de una medida concreta sin hacer antes un análisis en detalle de la realidad estamos convencidos de que no va a lograr atajar el problema

abiertos seguramente más accesibles y más fáciles sobre todo para las personas jóvenes con la habilidad que tienen tan enorme en el uso de las nuevas tecnologías

a estas nuevas formas de jugar por eso nos parece que es necesario

la realidad en relación con el juego y por eso la enmienda de totalidad que en su momento presentamos a su proposición de ley pues va en esta línea en la conveniencia que se elabore un estudio

con especial consideración a su afección a las personas menores de edad

concretas pero mejor orientadas a fin de avanzar en el desarrollo de un juego

formas de juego a la que se enfrentan hoy en día las personas jóvenes pero

el gobierno vasco continuará como viene haciendo hasta ahora realizando diferentes actuaciones y actividades

muchas gracias señora presidenta señora consejera señoras y señores parlamentarios buenos días a todos partimos de un punto

efectivamente el juego puede convertirse en una adicción para muchas personas una adicción con consecuencias

para la salud para el patrimonio para las relaciones personales familiares profesionales o las relaciones sociales de muchas personas ese peligro está ahí está encima de la mesa y no es un asunto que esté controlado todo lo contrario está creciendo

crece y por eso es necesario que tomemos medidas para proteger a los más vulnerables en este caso que son nuestros menores nuestros jóvenes y hay que tomar medidas hasta ahí estamos todos de acuerdo las soluciones yo no comparto ni las que usted nos propone ni las que nos proponen

los grupos que apoyan al gobierno por

cuestiones diferentes y situaciones completamente distintas entiendo que una cosa son

y la incidencia sobre la juventud es completamente diferente las medidas de control

serían un pequeño parche para un problema que es mucho más grande un joven no puede comprar una cajetilla de cigarrillos o una botella de vodka a través del móvil a una empresa que tiene sede

sin ningún tipo de control esa medida que sí que serviría

posiblemente no son solamente ese tipo de máquinas que están en los establecimientos

las tragaperras realmente a los jóvenes les afectan menos y les atraen francamente poco porque el juego que realmente les atrae es al apuesto deportiva eso es lo que está de moda entre ellos y eso es lo que está haciendo mucho

hay que tomar medidas serias y aunque hoy no vamos a compartir la propuesta que nos trae lo hacemos con la tranquilidad de que han abierto o ha reabierto un debate en el que seguramente vamos a llegar a acuerdos unánimes en esta cámara para tomar medidas posiblemente

más contundentes y más efectivas ante un problema que está creciendo y que está afectando profundamente a nuestra juventud efectivamente está de moda apostar y nos lo están metiendo por los ojos pero ya el problema no es solamente la máquina de apuestas que está en locales de hostelería yo creo que el problema está en

o el juego directamente a través de los teléfonos móviles o de los ordenadores no solamente de las maquinas en locales de hostelería de fácil acceso eso está regulado y como está regulado lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla la legalidad vigente por eso tampoco comparto señora otalora propuesta que nos hacen desde el gobierno efectivamente es una solución para otras iniciativas y para un debate de conjunto pero lo que tenemos que hacer es exigir

la señora consejera de seguridad en la cámara en estos momentos porque efectivamente lo que no está funcionando son las medidas de vigilancia y control hay que hacer más hay que llegar más lejos todavía porque efectivamente la legislación no se cumple y tampoco se va a cumplir aunque utilicemos

el dueño y responsable del local de hostelería que vende tabaco a menores que vende alcohol a menores va a seguir permitiendo con o sin mando que los menores jueguen el dueño responsable no lo permite

a los menores para que no lleven a cabo prácticas para las que no están autorizados por la edad que tienen por eso estamos en contra

sustentan al gobierno como la de la proponente de la iniciativa y a la señora garcía le tengo que decir que tampoco comparto

medidas en las que podemos estar de acuerdo pero que no poco tienen que ver con

no creo que debamos limitar los derechos de determinados hosteleros por dónde tengan puesto su local porque tengan cerca o lejos un centro deportivo un centro educativo o un centro escolar no creo que debamos limitar los derechos de los hosteleros la limitación de

y hay que mantener una serie de distancias de determinados puntos o entre los propios locales

pero en las localidades más pequeñas en nuestros pueblos es prácticamente imposible de cumplir y adoptar medidas de ese tipo llevaría a tratar

ellos los mismos derechos y el tema de la publicidad evidentemente es un problema pero se escapa de nuestras competencias nosotros no podemos prohibir que los equipos vascos tengan determinados los equipos deportivos vascos tengan determinados patrocinios

dejaríamos en un lugar desigual pero entiendo que todo esto tiene que ir a un debate mucho más amplio en el que estoy seguro que vamos a llegar a medidas
de acuerdo y de consenso y que serán aprobadas por las unanimidad de la cámara muchas gracias eskerrik asko ruíz de arbulo jauna

estamos de acuerdo que hay que tomar medidas es una pena porque

todos los grupos hemos trabajado desde el consenso porque somos conscientes de la problemática que tenemos pero bueno en este caso nuestra pnl de hoy no se va a aprobar tanto el señor prieto como la señora otalora nos hablaban de que ya

herramientas pero bueno tendremos que pensar por qué no funcionan como deberían de estar funcionando porque según esa encuesta de prevalencia

por lo tanto no se está haciendo del todo bien y les tengo que recordar que la ley de adicciones se aprobó en el año dos mil dieciséis y todavía está sin desarrollar no ha habido más que un decreto

estructural pero no se ha entrado al fondo de lo que recoge esa ley está sin desarrollar entonces claro hay que tomar

registrada para hablar de esto de manera general pero es que se pueden hacer estudios podemos ver qué realidad tenemos con más concreción porque habrá datos veremos qué medidas se tomas pero es que

es tan fácil de ver es tan fácil de ver una máquina de apuestas deportivas en un local

los menores tienen prohibido apostar por ley estamos garantizando lo estamos garantizando

que en sus manos está que un menor apueste o no pero es que muchas veces cuando un local está lleno pues es fácil es relativamente fácil que entre varias personas vayan a la máquina

puede ser una medida un parche como decía el señor

seguramente que a ustedes como a mí cuando se les pincha la rueda del coche la cambiamos aunque tengamos que pasar la itv bueno pues aquí tenemos una rueda pinchada

claro y notorio lo que está ocurriendo vamos a tomar medidas es fácil estudiémoslo por lo menos estudiémoslo luego ya pasaremos la itv y me sorprende porque es que el gobierno está estudiando esta posibilidad la está estudiando no me lo invento

cadena ser vitoria el director de juegos y espectáculos el señor urrialde en una entrevista

desde el gobierno vasco también estudian implementar el bloqueo a menores de las máquinas de apuestas deportivas de los bares como se hace ya

aunque reconoce el director de juegos y espectáculos que resolver ese problema es complicado sucede

de un bote que hacen los menores es una situación compleja

este problema bien pues por esa regla de tres

porque lo hacen a través de mayores de edad les pagan ponen un bote y compran los mayores bueno pues dejémosles que compren alcohol verdad

dejémosles que compren alcohol total como lo van hacer luego a través de mayores de edad pues en este caso igual no nos parece una propuesta con mucho sentido y luego nos decía el señor urrialde en este sentido desde el gobierno vasco consideran que resultan más eficaces las campañas de concienciación que realizan todos los años en institutos de euskadi

en una adicción a los juegos de azar bueno pues según el director de juegos y espectáculos habrá que decirle a la señora beltrán de heredia que la ertzaintza nos deje de multar que no ponga radares en las carreteras

según el director de seguridad verdad bueno nosotros siempre hemos apostado eh bildu siempre ha apostado por un juego responsable siempre ha apostado

de riesgos y daños pero es que en este caso creemos que hay que poner no prohibiciones limitaciones creemos que hay que limitar porque el problema como decía está

medidas de índole legal pero como he dicho tenemos una proposición no de ley registrada para hablar de todo eso y de más se puede hablar del desarrollo de la ley se puede hablar de los planes de adicciones lo que está claro es que hoy tenemos una realidad clara

que encender los pilotos rojos que tenemos que hacer algo es una medida sencilla transitoria si quieren pero absolutamente realizable y creemos que mediante esta medida pues podríamos

que podríamos evitar que menores como están hoy en día enganchados es una pena no solamente por ellos por las familias por todo lo que esto conlleva es una pena como decía se ha roto este acuerdo que siempre ha existido en esta cámara pero bueno

eskerrik asko mahaiburu andrea la verdad es que estoy confundida

escuchando las intervenciones del resto de grupos estamos todas de acuerdo en que existe una problemática existe una realidad además está aumentando que todos queremos abordar y que todas queremos solucionar que además afecta de forma específica y de forma mucho más grave a las personas jóvenes

no vamos a llegar a un acuerdo y no vamos a llegar a un acuerdo porque la iniciativa que presenta la señora blanco

y que por supuesto aceptamos que nuestra enmienda sea votada por puntos supone una serie de medidas

concretas que ustedes han decidido que a pesar de estar de acuerdo

y digo ustedes me refiero a la señora otalora y al señor prieto porque el señor arbulo

no le gusta nada pero no propone tampoco nada no me ha quedado claro qué es entonces lo que usted quiere porque es verdad que existe otra iniciativa registrada

donde vamos a poder debatir dentro de un marco legal y donde vamos a poder todos los grupos ir aportando en un tema que entiendo que de base sí que tiene consenso

hay una falta de voluntad políticas que a mí de verdad me sorprende

los partidos que sostienen al gobierno bajo mi punto de vista está basada una vez más en generalidades en una falta de concreción una vez más no sé por qué además se sale por la tangente se busca aprobar

en sus discursos he oído hay medidas hay leyes claro que hay medidas y que hay leyes hay medidas y hay leyes para todo ahora es cómo las aplicamos y cuál es la realidad

hay una nueva realidad entiendo que tiene que haber nuevas medidas que se adapten al crecimiento

muy sencillo ustedes la verdad que en su enmienda hablan de reducir de riesgos asociados pero en ningún caso concretan

la verdad lamento que no podamos ponernos de acuerdo en algo en lo que todos estamos de acuerdo en base pero

no somos capaces con el tema además con la cuestión de la publicidad es verdad que hay una serie de competencias que son estatales es verdad que hay una serie de cuestiones que están reguladas pero también es verdad que el gobierno vasco

subvenciona actos con dinero público donde se podría limitar un tipo de publicidad y hay espacios

que se podría limitar esa publicidad creo que a veces es muy fácil quedarse por encima y no entrar en lo concreto y creo que estaríamos porque no es solo una cuestión

de acuerdo o que esté dentro de lo que pensamos los grupos parlamentarios es algo que está en la sociedad es algo que está en los colectivos y que están exigiendo asociaciones de vecinos colectivos en contra

era una buena ocasión para de verdad partir de este acuerdo y después en otras iniciativas

la señora blanco u otras podamos tener un debate en profundidad y un debate serio creo que hemos perdido una oportunidad mila esker eskerrik asko garcía

que estamos todos los grupos totalmente de acuerdo con el fondo de esta realidad de esta cuestión de la problemática que existe y ha quedado muy claro cuál ha sido la postura

en este caso concreto hemos dicho que por supuesto apoyamos cualquier iniciativa o toda iniciativa que vaya enfocada a avanzar en este punto sin ninguna duda pero no

hemos dicho claramente y hemos expuesto claramente la razón por la cual no se ha apoyado este punto concreto que estamos hoy debatiendo no simplifiquemos las cosas hemos perdido una oportunidad yo creo que la oportunidad está ahí esta puesto el debate sobre la mesa tenemos desde luego mucho camino que recorrer estamos todos conforme con ello y yo creo que tenemos oportunidad para hacerlo pero no en base a una medida concreta que se ha propuesto hoy aquí que bueno que puede ser mejor o peor que otra pero en todo caso es una medida que de forma arbitraria

me pareció una cosa asimilándolo a las máquinas de tabaco aparentemente parecía una cosa que podía ser hasta sencilla no

en la medida que se propone yo creo que para nada es asimilable la situación de estas máquinas con lo que es una máquina de tabaco cuando una persona va a una máquina a comprar un paquete de tabaco va a comprar un producto va a hacer un acto muy concreto en un momento muy concreto cuando una persona va a una máquina de este tipo pues

con unas cantidades económicas indeterminadas imprecisas

multitud de interrogantes de difícil respuesta

cómo evitas que una persona mayor de edad active esa máquina y no vaya detrás un menor de edad

un análisis más en detalle en conjunto de cómo está la realidad de cómo está la situación en qué

más que fallando o en que ámbitos es mejor reforzar la actuación que se hace que no empezar a decidir o a tomar decisiones respecto a analizar una medida concreta

de conjunto y en todo caso además también en relación con esta medida concreta ya que estamos hablando de ella

sí que es verdad y lo hemos dicho es algo que está cada vez proliferando más o se llega a poner alguna medida que de alguna forma frene

pues aparentemente puede ser una buena idea como digo pero claro en la práctica esto qué va a suponer seguramente lo que vas a hacer es derivar el hábito hacia otros ámbitos hemos hablado aquí también en varias ocasiones el mundo online el mundo de internet que es tan amplio y tan grande

aparecen continuamente multitud de páginas ilegales es bastante difícil poner control en ello con lo cual creemos que lo que hay que hacer es intentar

de la inspección totalmente de acuerdo habrá que avanzar también en este ámbito

por qué no soluciones tecnológicas en un momento determinado pero con una visión más global más amplia que nos permita conocer bien la realidad que tenemos actualmente y poder determinar dónde poner el foco de atención hacia qué medidas concretas habría que derivarse para realmente

conseguir avanzar en lo que queremos pero no empezar a dar pasos hacia una medida concreta sin ese análisis global que nos permita tener una visión que nos ayude mejor a poder avanzar en esta situación

señora garcía no me he debido explicar

lo que desde nuestro grupo compartimos es la visión sobre el problema que tenemos lo que no compartimos son las soluciones que se han puesto encima de la mesa

soluciones que se ponen encima de la mesa ni como solución temporal ni como parche es que va mucho más allá hay que controlar de alguna manera que los jóvenes caigan en ese tipo de adicciones por eso antes lo ha comentado creo que ha sido el señor prieto creo que sería muy importante la presencia también

evitando que los jóvenes entren a jugar a una máquina de apuestas a un bar no conseguimos absolutamente nada porque los jóvenes se bajan la misma aplicación que tienen en la máquina del bar al teléfono móvil y juegan desde el teléfono móvil y eso no lo podemos controlar con un mando a distancia es mucho más complicado es un mundo muchísimo más complejo

pero sí tenemos que exigir medidas de vigilancia y de control es fundamental

el problema es que se está permitiendo la entrada no solamente en los locales de hostelería donde hay máquinas para que los jóvenes jueguen sino en los propios salones de juego donde tienen terminantemente prohibida la entrada y se está permitiendo

extremándolas haciéndolas mucho más fuertes mucho más continuas y con sanciones económicas importantes si se activa ese sistema conseguiremos de alguna forma

que tendremos que atajar en otras iniciativas en otros estudios que aunque la ley sea muy reciente el mundo de la apuesta deportiva el mundo del juego y especialmente entre los menores desde el año dieciséis a fecha de hoy ha evolucionado tremendamente igual tenemos que darle también
una vuelta a la legislación que se ha dado en este parlamento muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

de enseñanza de nuestro país el envoltorio de estas infraestructuras educativas que si son seguras que si son óptimas son factores que influyen y mucho en la educación de nuestro alumnado

garrantzitsuak estoy seguro que los aquí presentes

elegir entre un centro con mejores instalaciones o un centro con peores

que si en algún momento tenemos que elegir entre un centro u otro entre un centro con mejores instalaciones o un centro con peores instalaciones entre un centro que tiene

que tiene un edificio en condiciones con calefacción con las ventanas nuevas que tiene en definitiva buenas condiciones u otro que no tiene accesibilidad que tiene deficiencias que tiene goteras o que como pasa en sopela hay módulos prefabricados para estudiar seguramente tengamos dudas a la hora de tomar esa decisión eta

de esta proposición era asegurar seguir asegurando mejorar y también señalar las deficiencias que tiene el sistema las

que todos y cada uno de los centros educativos en euskadi se da enseñanza en condiciones óptimas en condiciones de seguridad y también de comodidad y también en condiciones

porque decía que estos espacios son los principales entornos en los que se da la enseñanza la enseñanza reglada y por eso los edificios las instalaciones

correctamente en perfecto estado de uso y de mantenimiento

pública y de calidad eta zergatik gaur hiru arrazoi nagusiengatik

y te diré qué valoras y es un poco por lo que traíamos también esta iniciativa en este momento el plan de infraestructura mil cuatrocientos dieciocho en un primer momento contemplaba una inversión

de euros pero tal y como la señora uriarte la consejera uriarte nos informó

había nuevas necesidades había elementos que no se habían tenido en cuenta y que había que reforzar

vista las necesidades que tenía nuestro sistema educativo de uno millón de euros para cubiertas

venía decir que las partidas que el programa

y el presupuesto que se había consignado para el plan no llegaba y esta partida se incluía la cubierta de patios

era una partida destinada a cubiertas de patios en centros docentes municipales y que respondía a una realidad constatada después de analizar las convocatorias

udalaguntza es decir ese plan estaba en vigor había necesidades nuevas y había necesidades nuevas que se incorporaban

es decir en los presupuestos del año pasado se crea esta partida porque con el presupuesto que se había consignado no llegaba arrazoi horiengatik eta

y en los presupuestos de este año lo que observamos es que la partida de udalaguntza se ha mantenido que la dotación presupuestaria del plan

de cubiertas de patio parece que desaparece que se integra en

general de infraestructuras tendremos que ver también qué partidas concretas relativas a cubiertas de patios están

y pedíamos estos aumentos presupuestarios no por capricho

de la enseñanza en euskadi lo tienen que hacer en entornos físicos adecuados suficientes y de calidad

no elkarrekin podemos sino las propias balanzas los propios informes

gobierno dicen que no ha sido suficiente hasta ahora y los propios números que algunos diremos ahora así lo demuestran la lista de

por qué nos han venido tantas de golpe en esto últimos años por el tipo y cuándo se construyeron

ese problema de eso se trata en la convocatoria de udalaguntza como decía quedaron fuera al menos

de presupuesto y la lista es larga y yo no tengo tiempo

para analizarla pero bueno tenemos un caso grave que lo vamos a tratar próximamente también como es el de los barracones o en de los módulos prefabricados que a mí me resulta indiferente

la terminología pero sí que estamos hablando de un entorno no adecuado para la enseñanza que es el que tienen

en sopela estamos hablando de la cubierta del patio de albiz de sestao que también vendrá dentro de poco al parlamento

de la situación que los portavoces y las portavoces de la comisión de educación

el lunes en twitter un profesor el colegio miribilla

un año y pico después de estar nosotros por allí volvía a subir fotos con todo el colegio lleno de cubos goteras falsos techos medio caídos en un colegio que es prácticamente nuevo y que ni el ayuntamiento de bilbao ni el gobierno vasco han sabido o no han querido arreglar es un colegio que necesita especial atención

de educación por las características que tiene ese colegio que es fundamental para garantizar que en algún momento logremos el desarrollo social y la integración social y el desarrollo también humano allí en el barrio de san francisco y las zonas bajas de miribilla pero quería

en su conjunto porque tenemos problemas en san adrián tenemos problemas en gallego gorria etcétera etcétera etcétera

que el resultado que no haya sido el que el colegio esperaba es un resultado bueno pues vamos a decir satisfactorio pero porque hemos tenido que hacer

por eso queremos y por eso décimos que es importante la evaluación del plan que

algunas medidas concretas además a través de las enmiendas y la transacción final entre todos los grupos para intentar evitar que

se hagan mal sino que tenemos que conseguir que desde un principio la obra se planifique y se desarrolle con garantías

también hay que decir que del plan inicial de esas casi doscientos actuaciones cerca de cincuenta por diferentes motivos se han dejado de hacer

behar dela por eso preparamos una propuesta de transacción que desde un primer momento pensamos que incluía la mayoría de los aspectos del resto de grupos y finalmente

al que hemos llegado no es evidentemente la propuesta inicial de elkarrekin podemos pero pensamos que los cuatro puntos que hemos acordado son fundamentales para partir

el nuevo plan y en eso seguiremos horrexegatik nik uste dut pozgarria del akordioa nik uste dut

ez da hau gertatzen eta bueno no sé si será el principio de una nueva amistad o no pero granito de arena para empezar el plan de infraestructuras diecinueve

el que tenemos en vigor lo dejamos encima de la mesa eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

transaccional y lo hemos hecho en el espíritu que expresaba aquí

vamos a ver si todos empujando ponemos esto en marcha pero sin duda cuando firmas una transaccional te quedan muchos

cosas que para ti son importantes te las dejas fuera del documento entonces aunque no sea más que para que consten en acta

sí que me gustaría expresarlas aquí vamos a ver nuestro grupo sabe

martínez que ya me conoce ha anunciado que lo diría nuestro grupo ha reconocido desde el principio yo creo que desde las primeras intervenciones

este gobierno lo ha tenido difícil lo ha tenido difícil por una razón la vuelvo a repetir en el año ochenta y dos

y se traspasan muchos centros y hablando de bilbao

que es que se le traspasaron centros que se habían construido durante la república unos centros

pero claro eran de la república y en gipuzkoa tenemos las famosas escuelas viteri que se traspasaron también y que eran

en todo gipuzkoa y además se traspasa en un momento en el que todavía estamos al final del baby boom con lo cual hay una necesidad de colegios

y se empiezan a construir en esos años ochenta y hoy estamos aquí y esos centros se han quedado

más los parches que hemos podido hacer a todos los que recibimos como parte de la transferencia se han quedado obsoletos son centros que tienen treinta años y se han quedado obsoletos estructuralmente habrá que cambiar calderas tejados electricidad poner fibra

obsoletos en cuanto a las necesidades que hoy en día tiene un centro desde las necesidades de accesibilidad que se van acometiendo sin duda hasta necesidades educativas pedagógicas

de crear un entorno pedagógico como el que ahora se exige y luego las necesidades desde luego de que en el comedor los niños no estén metidos

de ochenta y tres decibelios todo eso son necesidades que surgen y a nosotros nos gusta hacer historia porque si vamos a lo inmediato

no contamos toda la historia no entendemos la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando y es una magnitud importante

año y medio fue en abril de dos mil diecisiete la consejera nos dijo el señor martínez que ya se había cumplido el ochenta por ciento del plan que estaba ya cumplido o en vías de ser finalizado

y año y medio después no tenemos una evaluación de ese plan y es que el tiempo nos va a comer y nos va a comer por qué porque miren

mírenlo como lo miramos nosotros es que de este año laborables no nos quedan ni veinte días

y la consejería en general de educación va a ser capaz veinte días de hacernos una evaluación del plan

bueno qué están esperando a poner el último clavo el día de año nuevo

no lo creo tendríamos que tenerlos aquí a veces se reprocha a nuestro grupo

pero miren en educación

desde luego alguien lo pondrá defender como nosotros pero más nadie porque el procedimiento administrativo supone la igualdad de los ciudadanos ante la ley

el tempo del departamento tiene que adaptarse un poco más al tempo de los sujetos sobre los que actúa en esa comparecencia

nos dijo contenta la consejera y probablemente tenía razones para estarlo que para el año dos mil

solo iba haber cuarenta aulas en módulos

y esos niños venían desde hace años en módulos

pero es que tenemos niños que han hecho toda su primaria en módulos o toda su secundaría

incluso un mandato que para nosotros pasa tan rápido estamos ya en el tercer presupuesto es la diferencia que hay entre un niño entre ocho y doce años

tiempo que es un tesoro para su formación

por el tempo no tenemos la evaluación todavía

y además vemos que el plan que ahora se cierra

de los que ya se ha hablado aquí se cerró en unos trescientos millónes de euros es el heredero del anterior plan

dos mil ocho dos mil doce que tenía setecientos millónes hemos pasado de setecientos millónes de euros a trescientos millónes de euros pero no solamente eso sino que en el documento que nos

de las infraestructuras que se iban a hacer con esos trescientos millónes pues no les miento si les digo que la mitad la mitad

esos que no se habían hecho con los setecientos millónes por favor pongámonos las pilas todos queremos tirar juntos del carro pero pongámonos las pilas y ahora

en el nuevo presupuesto que se presenta que el plan ese plan de infraestructuras que todavía no conocemos pero que alguien habrá tenido que calcular algo porque han puesto cuarenta y cinco millónes me imagino que para poner cuarenta y cinco millónes traerán causa de una reflexión de un primer análisis con cuarenta y cinco millónes señores no hacemos nada

es que gastar el dinero es difícil ya pero miren nos dijo que iban a meter también el arreglo de los comedores la cubierta de los recintos exteriores

nos lo dijo cuando nosotros reclamamos que quitara ruido a los comedores pues mire la intervención

obras le va a pedir que se consigne todo el dinero luego lo pagaremos poco a poco con certificaciones de obras pero si viene aquí

el interventor le va a decir para licitarla consígname ese dinero ese dinero desaparece y estamos hablando de que tenemos

unoseiscientos centros en los que vamos a tener que actuar de verdad

señora consejera preséntenos el próximo plan de infraestructuras

dinero de esos cuarenta y cinco millónes no llegamos a nada y habremos perdido todo un año del siguiente plan

quiero decirles que nosotros nos volvemos a mantener en que la escuela pública tiene que competir

y para competir en calidad necesita unos centros de calidad y unos centros de calidad se consiguen con los planes de infraestructuras en fin les agradezco que me hayan escuchado porque todo eso es lo que se nos quedó en el tintero al llegar

a esta transaccional muchas gracias eskerrik asko bengoechea

vamos a tratar un tema en el que afortunadamente quiero empezar a destacarlo

novedad digna de mención especialmente en un tema

sobretodo viniendo de una comisión de educación la semana pasada donde también aprobamos dos propuestas también por unanimidad

como este como el de educación creo que es un elemento a destacar y siempre que prima la responsabilidad y el sentido común

cosas interesantes y de otra forma no se pueden abordar temas que para una sociedad son troncales como es el tema de la educación

y en cualquier otra parte en cualquier caso voy a empezar por felicitarme cada uno ha hecho una parte de renuncias a sus planteamientos previos como ocurre siempre cuando se hace un pacto y nos hemos quedado con el territorio común con el mínimo común denominador

lo que venga a partir de ahora en el mundo de la educación en concreto con el nuevo proyecto de ley pero vamos a lo que tocaba aquí concretamente lo que presentaba podemos que era un tema de inversión destinada a los equipamientos la mejora de los equipamientos escolares públicos

material y tangible con el que se encuentran los alumnos y los docentes no solo son los espacios la primera toma de contacto también las infraestructuras el material que tenga la escuela y el equipamiento escolar con el que cada centro está dotado y en este entorno

de todos los alumnos y alumnas y este entorno debe estar

en óptimas condiciones para poder desarrollar lo que se pretende que es una educación de calidad y que garantice la igualdad de alumnos ante las necesidades educativas que tengan como ya se ha anunciado aquí tuvimos la comparecencia de la consejera de educación en abril

y en esa comparecencia la consejera expuso el nivel de cumplimiento del programa de mejora de infraestructuras en centros de enseñanza pública dos mil catorce dos mil dieciocho de aquella comparecencia lo que se extrae es que de las obras recogidas en dicho plan de infraestructuras hasta esa fecha un ochenta por ciento habían sido ejecutadas

siendo tramitadas por parte de la administración ambas categorías entraban dentro de ese ochenta por ciento en esos casos hay que tener en cuenta que muchas veces se trabaja con previsiones presupuestarias o probabilidades puesto que a lo largo de los cursos escolares pueden surgir

lo que vas a necesitar y luego la realidad te puede obligar a hacer modificaciones como ya ha recordado la señora bengoechea en este propio plan hubo que hacer ampliaciones presupuestarias porque las previsiones iniciales quedaron desbordadas y no le quepa duda de que en todos los presupuestos

en las previsiones siempre hay un margen para recoger imprevistos necesidades nuevas a las que hay que dar respuesta y en esta legislatura ya hemos sido participes de alguna de ellas como recordaba el señor martínez la semana pasada tuvimos la oportunidad de visitar una de esas infraestructuras que ha tenido

de cubrimiento del patio del colegio luis briñas de santutxu empezó con un proyecto el proyecto se fue ampliando

en la que había complicaciones urbanísticas por la densidad del propio barrio en la que existían también condicionantes urbanísticos de todo tipo y además

pero al final se ha llegado a una situación satisfactoria por ambas partes por qué

se ha conseguido llegar a un consenso básico se ha cambiado una parte importante de lo que inicialmente se solicitaba por parte del centro porque fueron surgiendo necesidades nuevas y la visita bueno fue una visita positiva en la que pudimos constatar

también estuvo el arquitecto municipal de bilbao que tenía mucho que decir en ese aspecto y creo que ese es el camino contar con la participación de la comunidad educativa

a las demandas y a la realidad concreta que se plantean por la comunidad educativa es importante señalar también algunos aspectos desde el año dos mil trece se han reducido

son todavía demasiadas es verdad y habrá que continuar con ese esfuerzo aunque se había establecido para ello un incremento de cuarenta y cinco millónes de euros

como obras menores y de esas hay muchísimas en todos los centros van dirigidas al mantenimiento de los centros

se ha ido aumentando todos los años en comparación con la inversión prevista en el programa general

el plan de infraestructuras debe realizarse con un trabajo previo que permita establecer las prioridades con un programa de actuaciones concretas y para ello es verdad es imprescindible hay que realizar una evaluación del plan de mejora de infraestructuras dos mil catorce dos mil dieciocho

lo que se ha hecho el grado de satisfacción que existe en lo realizado y el cajón que todavía queda de peticiones y necesidades que no se han podido acometer

sino nuevas necesidades que han ido apareciendo en este periodo

y las necesidades pueden ser muy variadas instalaciones de todo tipo acondicionamiento de instalaciones mejora de las instalaciones nuevas instalaciones o ampliación de los centros

o por movimientos migratorios que de todo hay y mi grupo considera que para garantizar una educación de calidad debemos ofrecer también entornos o instalaciones de calidad con equipamientos que hagan más fácil

introduciendo también las nuevas tecnologías y esto a veces también significa adaptación de los centros escolares que a su vez dispongan de herramientas para llevar a cabo su aprendizaje todo esto debiera de contemplarse en un plan de infraestructuras y que garantice la igualdad de oportunidades por supuesto en todos los centros escolares públicos del país vasco y esto de hacerse para adecuar las infraestructuras educativas a las nuevas sinergias que se puedan producir que las habrá con toda seguridad

por proyectos educativos que cada vez cuentan con más tecnología y es necesaria adaptarlo a los centros escolares

a tener en cuenta por el departamento y a tener en cuenta por tanto en los presupuestos y todo ello para que nuestros alumnos y alumnas puedan competir con competencias reales en un mundo globalizado en cualquier caso hay coincidencia creo

eso se ha podido plasmar en esta enmienda que se va a aprobar por unanimidad lo cual es importante y solo esperamos que esto establezca un camino a seguir
a partir de ahora no solo en este sino en otros campos en un elemento para nosotros troncal en cualquier sociedad como es la educación eskerrik asko pastor jauna

gehiago ehun eta hamabi koma sei miloi euro gehiago dime en qué inviertes y te diré lo que valoras zihoen

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señoras señores consejeros señorías muy buenos días vamos a hablar de

a que ha dado lugar de encuentros y desencuentros en esta cámara y del futuro de la legislatura es el futuro de euskadi pero es el futuro

no les voy a fatigar demasiado con los antecedentes que son conocidos por parte de todos

a poco de arrancar la legislatura para retomar los trabajos de la ponencia de autogobierno que había venido reuniéndose y escuchando a distintas personalidades del mundo jurídico político etcétera

no había alcanzado ningún fin pero se decidió retomar y presuntamente se nos dijo que este iba a acometer o lo que se quería hacer allí era una reforma del estatuto

y creo que tampoco las intenciones se venían ocultando ya se hablaba de que lo que se quería dar lugar

un nuevo estatus para euskadi

naturalmente debía ser radicalmente rupturista con el estatuto de gernika una superación del mismo y por tanto abocaba

a los vascos de álava bizkaia y gipuzkoa durante todas estas décadas sino una nueva acción una cosa distinta y además que necesariamente tenía que

el ámbito constitucional no obstante se nos exigió mucho en que la pretensión es que

alumbrara un texto o una propuesta que tuviera unas características fuera legal

y de acuerdo entonces también con la constitución y sus previsiones y que obedeciera a un acuerdo entre diferentes la ponencia ha alumbrado una cosa que no tiene nada que ver con esto ni es legal porque desborda claramente

y tampoco responde a un acuerdo entre diferentes es una visión exclusivamente nacionalista de la vida el acuerdo solamente incluye a bildu

en el parlamento vasco para poder impulsar una reforma de este tipo todo el mundo sabe y a nadie se le oculta que si esto se transforma

no hay ninguna posibilidad de que tenga absolutamente ningún recorrido porque efectivamente violenta los límites constitucionales

pero en la ponencia ocurrió algo el pnv compró la tesis de bildu

tienen su coherencia y lo manifestaron desde el primer día y lo que pidieron fue que en esa ponencia de autogobierno no se fijara más límites

mayoritaria de la sociedad vasca que son la que entienden que ustedes representan en esta cámara y por tanto

las bases nos cuentan que existe un pueblo vasco no se afirma por qué razones se dice tiene todas las características de un pueblo que tiene derecho a tener su propia soberanía y que por tanto tiene una soberanía originaria que ahora quiere

comprende no solamente los tres territorios de la comunidad autónoma sino también

la rioja todavía no se había metido pero supongo que ahora podemos empezar a hablar también de eso no sé si es el ámbito donde se habla el euskera

veamos exactamente qué recorrido tienen estas bases esta manera etnicista de ver las cosas

no se quiere hablar de esto en europa fíjese hay gente que habla alemán en bélgica en francia en italia

de una base étnica de un pueblo alemán por los que hablen alemán o tengan cultura alemana hace más de sesenta años

porque ignora muchas otras cosas y por tanto yo rechazo claramente que pueda haber una base étnica para la constitución de comunidades políticas o que ese sea un criterio que tengamos necesariamente que seguir cuando ya no lo sigue nadie hay más gente que habla español o que es de cultura española fuera de españa que aquí y

mucha más gente habla en inglés que los que viven en el reino unido o hablan francés que los que viven en francia por tanto el rechazo que pueda haber a una tesis en el origen del pueblo vasco y en su soberanía y me parece una idea antigua y peligrosa como casi todas las ideas

de las bases no solo eso porque luego se nos va aclarando aunque la soberanía pertenece al pueblo vasco que es el que se ha descrito solo la pueden ejercer o se predica de los que son vecinos de la comunidad autónoma esto es lo que se dice el resto del pueblo vasco

en fin la soberanía la autodeterminación y la idea luego de usar la terminación para confederarse como

o para proclamar la independencia como desearía bildu eso solo lo pueden hacer los que sean vecinos de la comunidad autónoma

que formamos parte de ese pueblo que es titular de esa soberanía originaria que todo el mundo ha de respetar y

en esa utopía nacionalista que se quiere construir habrá nacionales y habrá ciudadanos

ese el nuevo estatus para los que no somos nacionalistas es como una ley de extranjería

nos va a reconocer derechos pero nos va a hacer extranjeros en nuestra propia tierra eso es lo que dicen las bases salvo que nosotros aceptemos que tenemos que ser nacionales

da igual donde haya nacido da igual el número de apellidos vascos que tenga da igual la lengua que hable

lo único importante es que sea nacionalista porque para ustedes solo son vascos los que son nacionalistas y por tanto esos van a ser nacionales y los que no son nacionalistas

es peor todavía que una base étnica es una base ideológica

sobre esas bases ustedes pretenden que se desarrolle el futuro marco de convivencia de los vascos niega profundamente la convivencia porque está basado sobre eso

la legitimación de su propuesta en una curiosa idea que nadie aplica tampoco en europa hace mucho tiempo porque dio también

y que las bases enuncian como que el respeto a la legalidad no puede provocar la vulneración del principio democrático lo cual quiere decir

y que nos rige en este ámbito el imperio de la ley hay algo más importante que es la opinión de la mayoría europa se ha construido sobre la vigencia del imperio de la ley

en europa se ha firmado que no hay una mayoría que pueda doblar una ley y que esa es la garantía de convivencia y es la garantía también para la propia paz en europa ayer pronunció un discurso importante el presidente del tribunal superior de justicia en la apertura del año judicial y recordó un par de ideas que son básicas

el imperio de la ley es la base de la construcción europea y del mundo que nosotros

y habló también de otro concepto que es el que ustedes manejan de decisionismo político que es efectivamente

lo decrete de esa manera y les habló de kant

y en qué medida esto puede respetar el imperativo categórico ustedes creen que la idea que propugnan es de aplicación a todos los demás

pongamos por caso que esta idea suya o esta visión del principio democrático es de aplicación a todos

en contra de la previsión de esa ley ustedes sí lo tienen por qué porque son vascos

yo quiero que piensen detenidamente en el lugar donde estamos porque nosotros somos ciudadanos europeos solo hay dos lugares en europa donde ahora se está defendiendo esta idea de que la voluntad de una minoría puede estar por encima dela ley que es en cataluña y aquí ustedes me dirán que hay una gran diferencia porque en cataluña no solamente defienden esa idea sino que la aplican y que la vía vasca consiste en que defendemos la misma idea pero no la aplicamos

para no aplicarlo es decir yo voy a fabricar una bomba atómica

pero no la quiero usar yo no soy como esos yo no voy a usarla la vía vasca es que yo lo tengo pero no lo uso

tengo esto tengo la misma propuesta que los catalanes pero no la quiero utilizar la tengo ahí yo soy bueno no la voy a utilizar

o aprieto o no aprieto o tenso o no tenso o si los catalanes independentistas

esto es lo que ustedes pretenden hacer y lo que ustedes de hecho están haciendo en la ponencia

cuyas palabras están llenas de bondad pero que tiene escaso don de persuasión

por no decir ningún don de persuasión ayer decía que estaba convenciendo a torra pero torra salió muy poco convencido

a mí tampoco me convence el lehendakari porque resulta que las palabra

y más bien son contrarias son contrarias a los hechos y nos ha hablado

es la externalización que es una cosa muy de moda llamar a unos expertos que vienen aquí a los que se les ha encomendado la misión señor egibar de encontrar la piedra filosofal es decir

absolutamente ilegales que tengan una apariencia de legalidad y de conseguir un consenso entre los grupos políticos que no han conseguido los políticos de la cámara

lo cual no deja de ser curioso es decir no hay mucha confianza tampoco en los propios políticos de esta cámara

eso no va a funcionar y no van a encontrar la piedra filosofal y mucho menos la van a encontrar en la disposición adicional primera de la constitución que es una cosa que verdaderamente me sorprende

de que el elemento decisivo para que el pnv no apoyara la constitución en su día fue su desacuerdo con la disposición adicional primera

pero en el ámbito de la constitución en la medida que son reconocidos por la soberanía que da lugar a la constitución y con las limitaciones que eso supone

yo he traído esta iniciativa a la cámara no para mostrar mi desacuerdo con las bases porque es conocido sino para

me parece que estamos en un punto en el que parece que iniciamos una legislatura nueva ha habido dos años de colaboración y de acuerdo y ha habido un hecho fundamental que es el cambio de estrategia del gobierno y su alianza

como el futuro de la organización política de la comunidad

sobre el que podría tomar decisión esta cámara y parecería que la legislatura empieza de nuevo y a mí eso me supone una dificultad política creo que también

en su ecuador desde luego la primera consecuencia es que impide que nosotros podamos dar sustento a un gobierno que defiende esas ideas

aliento y que podamos allanar el camino para que se pueda recorrer esa vía vasca

quiero decir con claridad para que nadie se llame a engaño que además la vía vasca no existe no existe

que existe y a dónde lleva claro lleva al quebrantamiento de la legalidad y a las consecuencias que ello implica eso no se quiere verdad la vía vasca no existe no hay ninguna vía al margen de la ley y

que andar a los engaños o andar con juegos como hemos andado la legislatura parece que empieza de nuevo y los socios estratégicos del gobierno se sientan en aquella bancada pero no les quieren ayudar porque entre ustedes recelan entre ustedes desconfían y ustedes compiten

qué juego es este qué táctica es esta por tanto a mí no me parece que todo eso no se tome en serio yo quisiera tomarme en serio la legislatura y quisiera

dar apoyo a un gobierno que tuviera capacidad de reforma y que pudiera mantener ese equilibrio de convivencia que ofrece

pero hoy tienen la oportunidad de retrotraer los trabajos de la ponencia al punto anterior porque no hay consenso porque no hay legalidad

como señala bien el señor martínez en su enmienda es una situación que el lehendakari ya calificó como fracaso estrepitoso entonces yo soy como soy

no lo consigo no me sale soy como soy pero somos posibilistas y pragmáticos y queríamos acordar

que por su bien por el bien del gobierno por el bien de la legislatura y por el bien del país vasco o del pueblo vasco como ustedes lo llaman voten a favor de esta

proposición y sigamos el camino de entendimiento que habíamos emprendido eskerrik asko alonso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

les decía efectivamente que desde el pleno de política general del veinte de septiembre no habíamos tenido ocasión de volver a debatir sobre autogobierno

lo que buscamos es llevarlo a un plano constructivo en esta enmienda recogemos literalmente las expresiones

por su partido el partido nacionalista vasco y euskal herria bildu y concretamente lo que hacemos es reflejar dos

el primero es que efectivamente euskal herria bildu y el partido nacionalista vasco tienen mayoría suficiente para aprobar en esta cámara un nuevo estatuto

a ningún otro partido y el segundo

sentimientos de pertenencia y de opciones ideológicas y políticas de nuestra sociedad no es ninguna excusa sino que es una realidad empírica que debe cuidarse

dela eta zaindu beharrezkoa den errealitatea gainera estoy convencido de que al grupo del partido nacionalista vasco le parecerá una enmienda digna de ser apoyada y que

eso sí yo les anticipo una cosa ojalá efectivamente voten a favor de esta enmienda porque estamos hablando de cuestiones más serias de lo que parece estamos abordando el futuro

de si ese futuro lo escribimos a muchas manos tantas como fuerzas estamos en esta cámara o si se hace solo a dos manos

estamos viendo si ese futuro va a ser compartido o si una parte de nuestro país

tenemos la oportunidad única en las últimas cuatro décadas de que alcancemos un acuerdo histórico histórico de verdad

que se haya visto en nuestra historia reciente un acuerdo que hable efectivamente de que somos una nación

no una homogénea y plana un acuerdo que blinde los derechos sociales de la ciudadanía vasca máxime cuando en el horizonte reaparecen

un acuerdo que haga de nuestra sociedad una puntera en igualdad entre mujeres y hombres un acuerdo puntero

un acuerdo que ponga en valor el euskera nuestra lengua propia

con iparralde y con navarra sin duda alguna sería el acuerdo más ilusionante

y a la ciudadanía vasca un acuerdo para sentirnos orgullosos y orgullosas de él y sería un verdadero error que se deje pasar esta oportunidad sería verdaderamente frustrante que cuando se dan las condiciones políticas y sociales propicias para llegar a un acuerdo de estas características algunos tomen otro camino el de un proyecto limitado a las fuerzas abertzales el de un proyecto que en vez de construir país

y sería bueno para el país que hoy el partido nacionalista vasco apoyase la enmienda que hemos presentado elkarrekin podemos

hace menos de dos meses azaltzen ari nintzen

que nuestra sociedad se enfrenta a retos de gran calado el reto de la globalización el reto del cambio climático de la pérdida de soberanía nacional en favor del capital trasnacional el reto de la igualdad entre mujeres y hombres el reto de las profundas transformaciones

van a traer al mundo del trabajo y la consiguiente dificultad para sostener un estado del bienestar si no es sobre unas bases radicalmente diferentes a las actuales

es esto lo que mayoritariamente debería estar ocupando los debates de autogobierno y del futuro estatuto porque el grueso de los artículos de ese estatuto hablaran de estas cuestiones si el nuevo estatuto es posible que ronde unos trescientos artículos o doscientos artículos vamos a tener

hablando de sanidad pública de empleo de servicios públicos de inclusión social de igualdad o de qué sectores económicos priorizar

llevamos desde el comienzo de los trabajos de la ponencia diciendo esto mismo esto mismo el momento de tomar una decisión de optar por un camino u otro ya se les agota

está cada vez más cerca y al juego de ambigüedades por el que

se le acaba el recorrido no da más de sí se lo he dicho antes creemos que es legítimo que ustedes quieran

tienen mayoría suficiente pero saben perfectamente que esa mayoría a dos en una sociedad plural como la vasca no es suficiente

un camino seguro hacia la fractura social hoy tiene posibilidad de resolver sus cuitas internas y de demostrar que en el partido nacionalista vasco la línea es una y no dos de que la línea es la del lehendakari y no otra
veremos qué votan o veremos si se atreven directamente a votar eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

útil a la ciudadanía reforzando y ampliando sus derechos para que siga garantizando en euskadi y para que se pueda llevar a la práctica con total seguridad jurídica porque respeta la legalidad y hago de entrada esta declaración porque la iniciativa del grupo popular es un doble trampantojo primero porque aparenta querer acordar un autogobierno mejor cuando lo que pretenden en realidad en el punto cero del debate segundo porque aparenta querer hacer un debate de autogobierno cuando su interés está en ratificarse en una excusa que han tenido que buscar para no negociar los presupuestos de euskadi para dos mil diecinueve y lo digo porque la iniciativa que hoy debatimos se anunció por el señor

en estos mismos términos con motivo del inicio de la tramitación presupuestaria y los socialistas no entendemos que el partido popular considere incompatible

desde hace dos meses y no lo considerase incompatible o impropio hace casi seis meses cuando un famoso veintitrés de mayo por la mañana

pnv bildu sobre el preámbulo de la actualización del autogobierno y unas horas después ese mismo veintitrés de mayo por la tarde

pacta el partido popular con el partido nacionalista vasco los presupuestos generales del estado para dos mil dieciocho es una situación cuanto menos pintoresca

hasta la presentación de esta iniciativa la posición del partido popular ha sido exactamente la de no considerar necesaria ninguna reforma del estatuto de gernika lo ha dicho el señor alonso hoy

alabando el mandato parlamentario de dos mil diecisiete por el buen criterio de incluir la alusión a los máximos consensos y al ordenamiento jurídico vigente ese mandato obtuvo

en su voto particular el que presentaron el mes de julio con respecto a la actualización del autogobierno la conclusión a la que llegaba el partido popular más allá del rechazo a las bases

a este asunto de la actualización del autogobierno nada de retomar trabajos echar el cerrojazo

y en septiembre proponen ustedes a un experto para participar en esos trabajos de articulación de la actualización del autogobierno de la articulación de las bases lo que resulta contradictorio con pedir que se paralicen dichos trabajos

porque los socialistas sí creemos que estamos ante una oportunidad para modernizar las herramientas competenciales que nos permiten mejorar la vida de la ciudadanía y además profundizar en la cohesión social de nuestra comunidad porque los socialistas sí hemos trabajado con intensidad

hemos estudiado las propuestas originales que llevaban los demás grupos parlamentarios hemos intentado incorporar voluntades que considerábamos que compartíamos de forma amplia

en otras comunidades y seguimos pensando que hay muchísimas coincidencias en torno a la ampliación de derechos sociales en la actualización de nuestras competencias

en nuestra adaptación a europa y los socialistas sí estamos convencidos de que podemos afrontar la actualización del autogobierno sin desbordar

sin transgredir el ordenamiento jurídico y los socialistas vascos damos una importancia extraordinaria a lo que supone el autogobierno que tenemos porque nos ha permitido vivir la mayor y mejor época de progreso que jamás ha conocido euskadi la que nos hace responsables de nuestra sanidad de nuestra educación de nuestra ertzaintza de nuestra renta de garantía de ingresos e incluso de nuestra radio televisión pública vasca e incluso también del concierto económico porque podremos estar más o menos de acuerdo cómo se gestiona pero son nuestras responsabilidades

por el valor que tuvo por el valor que tiene y por el valor que debe seguir teniendo como pacto de convivencia en una sociedad vasca de una extraordinaria pluralidad extraordinaria por su diversidad y extraordinaria también por la riqueza que esa pluralidad supone

ni debe despreciarse en el trabajo que nos queda por delante por eso los socialistas discrepamos de las bases pactadas y tenemos una propuesta que la presentamos por registro

porque la mayoría ha querido buscar una síntesis nacionalista en lugar de una síntesis de consensos amplios y plurales nuestra intención era

que pretendíamos articular con los aspectos que singularizan el autogobierno de euskadi y con su encaje legal y constitucional en el proyecto compartido con españa y con europa queríamos que desde el frontispicio del nuevo pacto se reconociera la pluralidad de identidades y sentimientos que existen en esta nuestra sociedad vasca

y mujeres en pie de igualdad queríamos que el preámbulo subrayara el valor del acuerdo político del estatuto en vigor que ha sobrevivido incluso al embate terrorista que destacara las singularidades ya admitidas y desarrolladas legalmente

en las disposiciones adicionales de la constitución y también en el estatuto de autonomía el concierto económico la cooficialidad del euskera o el derecho civil vasco en definitiva ese preámbulo debía definir lo que queremos ser a partir de lo que hemos sido pero lo que se ha acordado entre el partido nacionalista vasco y bildu

hemos sido en nuestra historia y lo hace además fuera del ordenamiento jurídico y los socialistas vascos queremos ser absolutamente claros y por eso hemos planteado la propuesta alternativa nuestro proyecto es un proyecto de derechos sociales no de derechos nacionales porque en los derechos sociales nos podemos ver representados todos en los derechos nacionales no

nuestro proyecto es federal no confederal y para bien uno u otro es necesario un cambio de la constitución además donde se debe hacer en las cortes generales nuestro proyecto se circunscribe a las personas y al territorio donde se puede aplicar que es a quienes habitamos en álava

política jurídica y legal e institucional

que ese preámbulo no era inocuo por mucho que se empeñaran en suavizarlo no lo era porque como explicábamos en ese voto particular los preámbulos y las exposiciones de motivos en las leyes son las que permiten luego interpretar los artículos que se desarrollan a posteriori

como se ha hecho que no derechos conduce a que el resto de su contenido se desarrolle bajo esa única visión nacionalista así lo primero que se cita en el título preliminar es precisamente la proclamación del derecho a la autodeterminación

y se confrontan peligrosamente el principio democrático y el principio de legalidad

con independencia de lo que se establezca en las reglas pactadas la mayoría nacionalista introduce además categorías de ciudadanía y hace la distinción entre ciudadanía

esta cuestión se deja muy claro que debe haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda la ciudadanía tendrá

pero quienes identifiquen como nacionales tendrán además otros otros que ya se verá en la ley que promulgue el parlamento vasco y seguimos esperando que alguien nos aclare en qué derechos distintos a los de ciudadanía para esos llamados nacionales además en las bases se propone un fondo de poder interminable para asumir competencias y poderes a la carta que se desarrollan en el resto del articulado

desde el preámbulo las intenciones nacionalistas en el fondo y en el procedimiento para fijar las bases lo que decidimos es que no íbamos a participar en ninguna forma de maquillaje el voto particular que presentamos los socialistas intenta ser un compendio de las coincidencias que nos permitirían ampliar ese pacto de convivencia

y el mayor periodo de progreso en euskadi un pacto para ensanchar los derechos de las personas adaptar las competencias a la realidad social distribuir esas competencias entre los poderes públicos vascos

reordenar las relaciones internas entre las instituciones para ganar en eficiencia y en eficacia en la prestación de los servicios públicos y en garantizar los derechos

e iguales con pluralidad de sentimientos con pluralidad de identidades

señorías requiere para no ser un fracaso de acuerdos mayoritarios pero también de acuerdos plurales requiere de claridad competencial

de solidaridad y de legalidad y los socialistas vascos vamos a seguir trabajando por esa actualización del autogobierno desde el convencimiento y la defensa de que es posible una propuesta de futuro para la ciudadanía vasca que pasa por esa pluralidad por la convivencia por la igualdad por la solidaridad y por la legalidad como no podía ser de otra manera

egon arte hay que reconocerle señor alonso que el esfuerzo es innovador

diez por ciento de los votos pide al parlamento que haga el favor de aparcar sine die los debates que no le gustan los acuerdos que no le gustan

algunos acuerdos sino todos los debates en los que ustedes no estén de acuerdo o quizás sea disolver el parlamento con el artículo ciento cincuenta y cinco de su constitución española con su interpretación particular para que solo se pueda debatir lo que a ustedes les gusta

y sigue en la cárcel y aquí en nuestro país y ase consumaron

hace algunos años ya intentaron colocar a mayor oreja y se tuvieron que conformar finalmente con patxi lópez en la lehendakaritza

centenares de miles de votos centenares de miles de votos

y palo saltándoselo todo y claro no entienden que alguien les diga que eso se ha acabado que aquí hay una sociedad madura que hay una sociedad moderna que aspira a ser libre y que no va a tolerar imposiciones ni vetos que es la hora de la democracia demokrazia dela balio duen bakarra quizás se apunten ustedes ahora a ese concepto tan críptico como es el de la transversalidad quizá sea eso

un único eje en la vida vasca solo les preocupa uno y lo mismo podríamos decir de sus socios del ciento cincuenta y cinco que es el de la identidad nacional y en esa obsesión identitaria por mantener la unidad de españa ustedes están dispuestos a cargarse las reglas más elementales

pero donde usted no ve un acuerdo suficiente le diré que este acuerdo cuenta con la mayoría amplísima de este parlamento que representa a la mayoría de la ciudadanía de araba

un acuerdo transversal transversal del todo que aglutina a hombres y mujeres jóvenes y mayores

nacidas aquí nacidas fuera gentes de la costa del interior gentes de los pueblos gentes que viven en las urbes porque los matices los ejes sobre los que se mueve la vida real de la ciudadanía vasca son mucho más ricos de los que ustedes desearían

con la unidad de españa se oponen a esto solo los que consideran que la democracia debe ser sacrificada en los altares de la patria creo que convendría seguir repasando

apocalíptico de que dar la palabra al pueblo produce división y enfrentamiento habrá que dejar claro

divide y enfrenta y lo dije en el pleno de política general quien niega la libertad no quien la pide

orain arteko defizitean ez jarraitzeko orain arteko defizit horretan jarraitu nahi ez badugu y entre estos derechos ocupa un lugar destacado el derecho de libre autodeterminación sí el derecho de libre

de derechos civiles y políticos el propio comité de derechos humano de la onu

de este derecho al subrayar que se trata de un requisito básico para que los derechos humanos individuales sean plenamente efectivos izan ere giza eskubideez ari gara

egunero lan egiten dugula euskal errepublika independente baten alde zalantzarik izan ez dezazuen pero ahora hablamos de la voluntad democrática del pueblo vasco de que esa voluntad democrática debe ser reconocida y respetada ese reconocimiento de la voluntad y de nuestro pueblo

que hemos aprobado en el parlamento vasco cualquier solución de futuro para el pueblo vasco pero también para cataluña o para otros pueblos con aspiraciones similares pasan por aceptar e integrar ese reconocimiento democrático

la propuesta del parlamento vasco plantea una relación entre los territorios vascos y el estado español efectivamente bilateral entendiendo por bilateralidad una relación de igual a igual

y una bilateralidad provista de los suficientes elementos de control

para los casos en los que no haya acuerdo los territorios vascos de esta forma contarían con todos los instrumentos de autogobierno todos los instrumentos de autogobierno

y solo desde el acuerdo previo bilateral podrían compartirse o cederse esos instrumentos en favor de estructuras estatales comunitarias o internacionales

no cumple todas las aspiraciones de euskal herria bildu pero hasta aquí impecable sería desconocer la realidad pretender que el camino que planteamos va a resultar sencillo más teniendo en cuenta qué estado tenemos ante nosotras pero la dificultad de la empresa no va a llevarnos ni a la inacción ni a la resignación

para una solución duradera sino que ofrece además vías políticas y jurídicas

esas vías pasan por una interpretación de los derechos históricos que tome como base al respeto a las reglas democráticas el principio democrático la decisión mayoritaria de la ciudadanía

madura es la capacidad de decidir que en esencia significa que la legitimidad democrática de una manifestación social clara y mayoritaria

o parcialmente el estatus jurídico político no puede ser desconocido desde parámetros

se impone la necesidad de abordar un proceso bilateral de negociación entre los poderes territoriales interpelados el uso de las vías represivas para impedir debates y para impedir encauzar democráticamente

supone un claro abuso de poder y pone gravemente en cuestión la calidad democrática de quien quiere hacer uso de dichas vías y una democracia de baja calidad

es hora creo que es hora de que el estado español se sacuda su incapacidad de siglos

a quien solo pretenden que se escuche su voz o a los que hacen cumplir el mandato de la ciudadanía azkenik eskerrak eman nahi dizkizut

y el tono agradeciendo el tono y el respeto pero cierta fijación en esto de las advertencias ya nos advirtió con aquello de con tanto empeño en el derecho a decidir pueden acabar perdiendo la capacidad de decidir que tienen

en el contexto del ciento cincuenta y cinco se nos dijo esto era aquel debate bien entonces cuando se te advierte

se te quita hasta lo que tienes se ve que el autogobierno tiene unos límites muga batzuk badituela eta

del rodillo nacionalista haciéndonos la aritmética de cuántos

y cómo los puede utilizar y se preguntaba conviene recordar estas cosas claro

el poder tiene límites usted dice mi voluntad puede cambiar la realidad quiero cambiar la realidad usted me tiene que dejar aplicar mi voluntad para el cambio de la realidad esa es la política

se inventó una regla que era la democracia liberal para que ese ejercicio de la voluntad tuviera limitaciones tuviera limitaciones que protegen los derechos

es muy antiguo es que yo no sé por qué hay que explicar las cosas más básicas y por supuesto la limitación fundamental es la ley

fuera del cauce de la ley este principio lo acepta todo el mundo no importa que usted tenga mayoría usted tendrá mayoría para hacer lo que la ley le permite hacer

en el ámbito de la ley entonces usted puede sumar número de parlamentarios pero hay otro número que usted no puede olvidar que son los ciento sesenta y nueve artículos de la constitución española

si cree que dios es omnipotente pero piensa que el pnv sí es omnipotente pues no es omnipotente

es un enorme avance el acuerdo al que han llegado y nosotros lo apreciamos antes nos decían si piensas distinto

o te pegamos un tiro hombre han avanzado mucho para ustedes es un gran retroceso porque ahora nos dicen te puedes quedar en el pueblo pero que quede claro que tú no eres del pueblo

yo le digo que nosotros deberíamos convivir en pie de igualdad aunque usted mande y tengan el poder

y que el juego de nuestras voluntades que son contrapuestas se arbitre bajo las reglas de la democracia y por tanto si la señora iriarte que a pesar de ser tan pequeño me hace tantísimo aprecio y yo no sé ya cómo reconocérselo porque habla mucho de mi humilde persona y de mi grupo

tiene la legitimidad reconocida por las leyes y porque esto es una democracia abierta

lo que no tiene el derecho es a destruir la unidad de españa sin considerar a los españoles que son los dueños de su país y que son los dueños de su unidad de españa y por tanto si usted lo quiere hacer tendrá que seguir el cauce para hacerlo

no se puede cambiar la constitución desde el parlamento vasco la

y el partido socialista muchas veces compran esa idea aquí se presenta una reforma del estatuto y nos hablan de una constitución federal manzanas traigo

porque montan una comisión en el congreso de los diputados y nosotros no avenimos para hablar de la reforma constitucional y el pnv si se presenta así les tratan a ustedes

a todos nos preocupa muchísimo si los socialistas son felices y más socialistas que nunca

porque tienen despacho me parece muy bien ese es su derecho a la felicidad

les da igual porque lo que están haciendo es mirar para otro lado no se dan cuenta que su socio de gobierno se ha ido con bildu

no se han percatado de eso no se sienten incómodos en esta situación señora corcuera

en la defensa del principio de legalidad pero dese cuenta de cuál es la situación y apriete porque no están ejerciendo el papel al que se ha iban comprometido de garantía

el pnv nos iba a echar al monte han trepado al monte están en el monte con esta gente ya están allí y por tanto no están ejerciendo ese papel y le pido que lo hagan con decisión y que aprieten ahí no debería venir yo para reñir

yo quiero llevarme bien con ustedes y lo he pretendido siempre en el mes de julio aprobaron esas bases fue en julio

y eso a mí se lo he dicho desde el principio al señor lehendakari que está ahora ausente me supone una extraordinaria dificultad política y yo no les pido que renuncien a sus ideas aunque algunas

incluso algunas me parece que son escasamente democráticas algunas ideas y lo he argumentado sus señorías o la persona de sus señorías y no les pido que las cambien ustedes pueden creer lo que quieran y ser nacionalistas y ser independistas o no

yo no quiero que cambien de idea yo quiero que cambien de posición

y no quiere que estemos en ese desencuentro y no quiere esas bases y además es que

lo que ha anunciado la señora iriarte con toda razón que hoy esas bases van a tener más legitimidad y apoyo porque aunque decía ella de una manera colateral

van a ser votadas también por el lehendakari urkullu muchas gracias eskerrik asko alonso jauna

si cogemos su contenido y vamos al fondo más allá de que usemos unas palabras u otras usemos unos términos u otros hay una determinada visión de país

una nación una lengua una identidad un derecho una historia esto sale mucho además en los apartados catorce y dieciséis que aparecen en el preámbulo

acuñó un término que era nacionalismo metodológico que se parece mucho

y esa concepción choca directamente con la idea de una sociedad plural la diferencia

entre euskal herria bildu y elkarrekin podemos es

un solo pueblo con una lengua una identidad y una historia y que la izquierda vasca en cambio somos capaces de afirmar que la ciudadanía vasca tiene elementos culturales singulares

sin cuestionar que en nuestra sociedad hay diferentes lenguas hay diferentes culturas hay diferentes identidades que lo propio lo nuestro no choca con la propia pluralidad de nuestra sociedad sin entrar a hablar de la archiconocida diferenciación

creemos que en nuestra enmienda podemos encontrarnos una amplísima mayoría de esta cámara son las palabras literales del lehendakari el pnv no debería tener inconveniente en apoyarlas de verdad el pse creo que tampoco

por lo que le he oído a euskal herria bildu creo que le gustan menos porque creen que no hace falta nada más que los votos que ya tienen que como he dicho es legítimo

el día veinte de septiembre en el pleno de política general hacerle una enmienda a la totalidad al lehendakari hoy tiene su grupo la posibilidad de decir

o de avanzar en ir aclarando de una vez entre ustedes cuál va a ser la posición final de su grupo

e inédita además creo que se queda corto para describir esta escena yo le decía en mi primera intervención

momento era hoy pero ya me ha dicho usted claramente que van a votar en contra yo no sé si el lehendakari volverá

quizás su grupo ha tenido la deferencia de no obligarle a votar hoy en contra de sus propias palabras

sinceramente van a dejar sin ninguna credibilidad a su propio lehendakari nada de lo que diga a partir de ahora tendrá la mínima importancia

sí gracias presidenta y como decía el señor egibar y desde la tranquilidad y desde la firmeza

de mejorar nuestro autogobierno que se pueden además ampliar los cimientos sobre los que construir un proyecto de futuro para euskadi en el que nadie se sienta excluido o excluida y además sin renunciar a los planteamientos que cada uno tenga

comentaba el señor egibar que se están poniendo amenazas y advertencias encima de la mesa por parte de diferentes agentes

a leerse el mandato del acuerdo parlamentario al que llegamos el veintiséis de enero

debía llegar esa ponencia en la articulación de un texto según las bases que aprobáramos en dicha ponencia para la actualización del gobierno pero

expresamente y otra más en lo que es el acuerdo de gobierno firmado entre socialistas y nacionalistas para la parte de más y mejor autogobierno también señala en el punto cuarto de la actualización del pacto estatutario se habla de que la ponencia establecerá o acordará la formula y el procedimiento más adecuado para la elaboración de un texto articulado que enuncie

respetando el ordenamiento jurídico ese es el acuerdo entre socialistas y nacionalistas por lo tanto señor alfonso alonso yo me alegro de que usted piense en nuestra felicidad o que le tenga preocupado nuestra felicidad no se preocupe de verdad no hace falta porque los socialistas no estamos pensando en nuestra felicidad propia y sí para algo estamos en un gobierno sí para algo hemos estado

la calidad de vida de la ciudadanía vasca para hacer proyectos sociales proyectos más integradores y más avanzados para eso estamos los socialistas en las oficinas y en los despachos y cuando no estamos formando parte de un gobierno

para que mejore esa calidad de vida de la ciudadanía vasca para eso en muchos casos nos hemos dejado también la piel e incluso la vida así que no se preocupe tanto

en segundo lugar decía también el señor egibar

el autogobierno o más autogobierno a quién puede estar perjudicando a nadie no hay nada malo en tener más autogobierno y mejor autogobierno cómo va a afectar a alguien dónde está el problema en romper las reglas de juego

otorgado en romper el marco de esa pluralidad y de esa convivencia

hay empieza a desencajarse y nos encontramos o se puede encontrar parte de la sociedad vasca excluida y usted lo sabe y usted lo sabe no es que sea un rancio debate entre constitucionalistas unionistas o nacionalistas no va por ahí usted sabe que no va por ahí lo dramático de esta historia

etapa de progreso en euskadi y que no somos capaces o yo no veo que podamos ser capaces con los planteamientos que hoy hemos oído en esta cámara para hacer que las generaciones futuras puedan encontrarse con un pacto de convivencia no igual mejor que lo que tenemos ahora y eso no se está dando

nos está excluyendo a una parte de la sociedad que formamos esa llamada pluralidad usted ha estado en un

que no que no es que sea cuarenta y seis cuarenta y ocho dos más arriba dos más abajo

plural plural en ideología y a mí me parece mentira tener que estar aquí hoy haciendo esta lectura cuando

fueron capaces de acordar en unos momentos además

que la que estamos viviendo actualmente fueron capaces con ideologías absolutamente diferentes de pactar ese pacto de convivencia de hacer ese pacto de convivencia del estatuto de autonomía del setenta y nueve y a mí me parece mentira

parlamentarias y parlamentarios no seamos capaces de articular esas bases comunes en lo que nos une para hacer ese pacto

nuevo estatuto ese nuevo autogobierno y actualizarlo con mejores condiciones eso es lo que me parece realmente penoso penoso y que estemos aquí para ver quién se lleva el machito quién es más

quién tiene esa mayoría que no se trata de mayorías que lo que hay que hacer es ser más integrador y si no hemos logrado conocer eso y hacer eso

no a costa de cualquier cosa no a costa de cualquier consenso por ser mayoritario es que no habrá merecido la pena haber estado tanto tiempo y tantos años trabajándonos una cuestión que podía haber encontrado un rumbo muy muy sensato en la política y en la sociedad vasca de hoy en día

antidemocrático utilizar la audiencia nacional y el tribunal supremo para criminalizar a los representantes de la voluntad popular

la utilización política de los tribunales ha sido una constante y para muestra la reciente sentencia del caso bateragune fue un juicio injusto señoras y señores usted

habla de que queremos más autogobierno efectivamente queremos más autogobierno y cómo cómo queremos más autogobierno cómo se consigue más autogobierno haciendo la lista de la compra del autogobierno que queremos y cómo implementamos ese autogobierno

ese mucha no ninguna porque todo el estatuto de gernika está cepillado o bajo

o desde luego rebajado hasta unos puntos insospechables no es lo que se acordó no es lo que produjo aquel acuerdo está clarísimo señora corcuera hablaba antes de tribunales y no me quisiera olvidar tampoco yo del señor ibarra que tendría que tener más clara su función institucional

para decir qué puede o no puede aprobar este parlamento igual no tiene interiorizado el principio de división de poderes a este parlamento

según la voluntad mayoritaria de la sociedad y al poder judicial y también al presidente del tribunal superior le toca aplicar las leyes que aprueba este parlamento le gusten más o le gusten menos el problema del estado español uno más de los que tiene es que el poder judicial también quiere dirigir la política y se erige

de la unidad de españa y de todas estas cosas y otro problema muy grave además es que cuando el presidente del tribunal supremo de justicia del país vasco

que ni se le ocurra aprobar el derecho a decidir lo hace rodeado de militares y de guardias civiles algo que no es menor porque todos sabemos lo que significa eso

ha leído el texto del acuerdo del gobierno de acuerdo hasta ahí pero eso sigue tiene una adenda ese texto ese acuerdo

porque va a resultar que el crucificado es él y no jesucristo no eso tiene una adenda

que también se iba a hablar del derecho a decidir del principio democrático del principio de legalidad y otra serie de temas muchos temas entonces habíamos convenido en que eso se iba a tratar aunque tuviéramos autonomía de posicionamiento es así y decía que

tener estos debates tan de otro tiempo pero

eso que se dice conflicto político o conflicto histórico

si se admite la existencia de un sujeto jurídico político pueblo vasco

esa es la cuestión de fondo el que hay una identidad prevalente además con un reconocimiento constitucional sobre otra realidad que es la nacional vasca

no reconocida como tal constitucionalmente si esa es la llave de solución en su caso para el determinado conflicto político y además decía otra cosa

de romper el marco o no romper el marco y esto lo voy a

o relacionar con algo que también decía alfonso alonso con tanta apelación a la legalidad la legalidad y qué pasa con el estatuto vigente

queremos restaurar lo dañado por supuesto recoger lo que queda por transferir y aumentar

con lo dañado y no cumplido cuántos años tienen que pasar esa es también una de las razones que

nos obliga a reflexionar y a determinar que un salto cualitativo en el nivel de relación se tiene que producir

a los que mantengan o compartan ese posicionamiento yo les animaría

la reforma del estatuto actual para derogar los artículos incumplidos porque entonces sí se acercaría a un estatuto legal y real por ejemplo pueden promover una modificación

del dieciocho del artículo dieciocho a la transitoria quinta también la referida al régimen económico de la seguridad por supuesto o la de las políticas pasivas con el artículo

en el sector público estatal banca y seguros etcétera etcétera hasta treinta y siete materias pueden ustedes promover una iniciativa de derogar

de qué estatuto hemos tenido qué voluntad política ha habido en los distintos momentos

gertatzen dena horregatik esaten dugu honek aldaketa bat behar duela que necesita un cambio cualitativo que no se trata tanto

o cambio de paradigma no se trata tanto de acordar

acordar con españa reconocimiento bilateralidad respeto esa es la cuestión es tan difícil articular un sistema de convivencia política una buena relación de vecindad política cada cual con las materias

siendo competente plenamente en con materias compartidas es tan difícil articular un sistema de convivencia política eso es lo que está proponiendo estas bases y principios

ese es el cambio de paradigma no se trata seguir en una relación subordinada acordando en españa sino pasar a un nuevo parámetro de relación y respeto y

aber aber aber en la primera